betetzeko asmoa eta falta da garraio publikoa garatzeko intentzioa no hay intención de construir la línea cinco de metro

es un problema de falta de voluntad no hay intención de construir la línea cinco de metro y no hay intención de cumplir las promesas que se le dieron a la ciudadanía y tampoco hay intención de desarrollar el transporte público

gertatu dena el gobierno propuso en dos mil seis hacer la línea cinco de metro no se le ocurrió a la gente

lo propuso el gobierno y después de doce años de cabreo

y de que la gente tuviera que crear una plataforma de que tuvieran que reunir cuarenta mil firmas para que se construyera la línea de metro sin saber ni cuándo

dinero ni con qué dinero la sospecha a día de hoy es que la línea cinco de metro se va a hacer lo ha dejado claro ayer el señor rementeria lo ha dejado claro el grupo nacionalista con la enmienda a esta moción no es un problema

de voluntad y no tener intención de construir la línea cinco de metro nos lleva a una costumbre cada vez más vasca que es la de no cumplir la palabra

se firman convenios que no se cumplen y vacíos de contenido real y empieza a ser una práctica habitual en este país a pesar de lo que se vende de la palabra de vasco o de vasca se juega con las expectativas se juega con su frustración con su cabreo con su rabia y se juega a que cada vez estén más desafectos de la política están jugando con la gente de galdakao con la gente de basauri con la gente de etxebarri

para luego no hacer nada eta zoritzarrez

la prioridad en este país sigue siendo el vehículo privado y el vehículo privado se lleva la intención política y no tiene nada que ver con el dinero a día de hoy el diputado general de bizkaia ya ha anunciado que se va a gastar doscientos millónes en

doscientos millónes de euros en cuatro kilómetros de una autovía a cincuenta millónes de euros el kilómetro ayer

creo que se quedaba corta es un desierto de oro es un desierto de oro que no llega ni al cincuenta por ciento del tráfico que en su día prometió

de euros ya la autovía más cara de españa a cincuenta millónes de euros el kilómetro y ahora vamos a meter otros doscientos millónes de euros más

mil millónes para la incineradora de zubieta hay dinero para lo que se quiere

ayer decía el señor rementería en un alarde de sinceridad que no todo tiene por qué ser subterráneo en este país y se refería a la línea cinco de metro

decía que muchas veces lo que se quiere hacer no es sostenible ni ambiental ni financieramente y se refería a la línea cinco de metro y sin embargo no se refería a la supersur

con una deuda de novecientos cincuenta millónes de euros para una sociedad que apenas tiene cincuenta millónes de euros de negocio anual baina elkarrekin podemosen bai

nuestro grupo elkarrekin podemos sí cree y apuesta por el transporte público y nuestro grupo elkarrekin podemos sí apuesta por dar respuesta a los problemas

y defendemos que la línea de metro sigue siendo vigente que la línea de metro cinco sigue siendo necesaria y que es necesario un compromiso real de las instituciones
en su favor gracias eskerrik asko

gracias señora presidenta egun on guztioi bien decía la

eh bildu que no se pueden hacer las cosas deprisa y corriendo pues hombre deprisa y corriendo precisamente con la línea cinco

en esta cámara efectivamente del metro de bilbao en este caso de la línea cinco este grupo ha presentado

dirigidas a completar las líneas del metro de bilbao tanto la línea cuatro que hace muy poco se debatió en esta cámara como la línea cinco que también no hace mucho se trajo trajimos a debate en esta cámara y

y decía lo de deprisa y corriendo porque hay algunas infraestructura que llevan mucho

en euskadi como el metro el metro ha tenido retrasos en todas las líneas en el dos mil doce por ejemplo tenía que haberse finalizado la línea tres y se finalizó cinco años más tarde y se dijo además que en cuanto se culminasen esas obras de la línea tres comenzarían con las obras de la línea cuatro y de la línea cinco

un informe de los propios responsables del metro estamos hablando hace siete años se definió cuál iba a ser el horizonte hasta el dos mil veinte y en ese horizonte ya aparecía

les trasladó eso mismo lo que yo decía que finalizada la línea tres habría que hablar con la diputación para continuar con algunas líneas en concreto con la que estamos debatiendo hoy la línea cinco además

más avanzado en todas sus fases previas esta línea aparece lo he dicho en muchas ocasiones en los distintos programas electorales aparecía

el desarrollo de las líneas cuatro y de la línea cinco pero en la legislatura anterior se hizo más bien poco

acuerdo de gobierno es verdad que allí hablan de diseño y planificación yo he hecho estas preguntas en muchas ocasiones y las voy a volver a hacer

llevamos hemos dedicado a planificar y a diseñar cuándo los vecinos de galdakao van a ver que las obras pasan del papel

a fuera del papel cuándo podrán ver el trazado de esta línea más allá de mirando en wikipedia ya desde el dos mil tres documentos como el pts ferroviario demandaba que se actuase en galdakao ha pasado por distintas tesituras y diseños primero eran dos paradas luego se añadió la de bengoetxe después el hospital de galdakao más tarde usánsolo para conectar con el valle de arratia

lo que hemos dicho en otras ocasiones parece

es decir que lo que se demandaba que se iniciase en el dos mil once diez años

dos años más tarde de que tenía que estar finalizada todavía continuamos estudiando y planificando la verdad es que es muy diferente las posturas de algunos partidos cuando están en el gobierno

o como estamos en la oposición perdón o cuando estamos en un año casi preelectoral en municipales y forales

de galdakao y recuerdo perfectamente que entonces el gobierno municipal del pnv se rasgaba las vestiduras por la falta de compromiso del gobierno vasco con el municipio se demandaba ya entonces que se fijase un cronograma y por supuesto se demandaba llegar hasta usansolo qué diferente lo que ha sucedido después verdad

en palabras de la consejera hay que estar a lo que se decida en función de la vertebración de los distintos medios de transporte cuando lo que se tiene que vertebrar es el territorio

cuando ya se ofertaba esta línea en el año dos mil diez hay que continuar con los estudios necesarios

el compromiso ahora debiera de ser no continuar como los estudios y con una planificación de cuándo y en qué condiciones podemos abordarlo

hecho ya la verdad es que nosotros no vemos que haya un compromiso

los partidos que sustentan al gobierno si en otros gobiernos solo se hablara de estudios y de planificaciones y nunca las obras se ejecutasen el municipio de galdakao tiene alrededor de treinta mil

afectadas por estas obras los vecinos y voy a citar palabras suyas cuando esto se trató en juntas generales hace un tiempo decían que sentían estupor los vecinos se han movilizado han hecho concentraciones y manifestaciones han recogido casi cincuenta mil firmas a favor de la línea a algunos

qué se va a hacer se va a desoír estas voces señalaba la consejera a lo que parece que también se ha unido eh bildu

pero hete aquí que sin que la autoridad de la movilidad se haya pronunciado la diputación de bizkaia ya ha anunciado a bombo y platillo la construcción de un doble túnel abajo la ría que unirá ambos márgenes que al margen

una buena infraestructura una infraestructura necesaria que incluso llega tarde porque nosotros como grupo la hemos demandado en muchas ocasiones la verdad es que no le quita al anuncio un claro barniz de autobombo de tufillo electoral

hay elecciones municipales y forales pero quien dice

pero después cuando haya que hacerse no vuelve a replantearse esta obra no vuelve a decirse que hay que hacer estudios y planificaciones que hay que vertebrar los distintos medios de comunicación una obra

además fuera del debate que sobre infraestructuras se está llevando a cabo en bizkaia

en su anuncio se ha dicho que se va a poder financiar sin aumentar el endeudamiento teniendo en cuenta el contexto económico de aumentos sostenibles de recaudación eso sí

qué quiere decir esto que determinadas infraestructuras sí pero otras no y la verdad es que

ya parece que no va a haber presupuesto para otras como por ejemplo la línea cinco y eso implica que el gobierno vasco pues como la diputación no pone su parte tampoco se tiene que preocupar por la dotación presupuestaria correspondiente y queremos volver a dejar claro el subfluvial de lamiako nosotros consideramos que es una obra fundamental pero completar

también y nosotros creemos que ya es hora de acciones de compromisos que vayan

reflexionado y planificado suficientemente hace diez años

nosotros creemos que son necesarias acciones que supongan ejecución de obras e infraestructuras que se plasmen una puesta por la sostenibilidad en una puesta por la línea cinco es hora de adquirir compromiso más allá

es hora de poner inicio a las obras y decir cuáles van a ser las fases de ejecución creo que es algo

los vecinos lo decían en su página web a la que antes me refería

sobre las actuaciones de los distintos grupos políticos algunos grupos políticos y de la diputación del gobierno vasco ellos solicitaban

para la ejecución de esta línea establecer los métodos de financiación y revisar las prioridades de los vizcaínos y vizcaínas en el transporte público señalaban que esto era lo que no se había hecho y que lo que se había hecho y cito textualmente era marear la perdiz

ha vuelto a pedir la prioridad de esta línea ha vuelto a pedir

ahora lo vuelve a pedir señala y lo compartimos que es el único municipio de

del metro con bilbao por tanto vecinos y equipo municipal solicitan lo que estamos solicitando hoy aquí lo que solicita

que creemos que es necesario un compromiso que creemos que es necesario que sea declarado una obra prioritaria

y de ejecución junto con previsión presupuestaria creemos que no es tanto pedir y creemos que después de tanto tiempo los vecinos de galdakao se lo merecen muchas gracias

debatíamos sobre el futuro de la línea cuatro del metro de bilbao

de la línea cinco una nueva apuesta un nuevo avance por la consecución de una euskadi más cohesionada mejor comunicada

más accesible y sobre todo más sostenible yo quisiera recordarles que este proyecto tal y como se ha dicho no es un proyecto que esté encima de la mesa desde hace pocas fechas es un proyecto que como bien

en la anterior intervención es un proyecto que viene ya de la época del gobierno del señor lópez que precisamente

esta línea y puso o sentó las primeras bases para lo que esperemos que en unos años sea una realidad por tanto desde el grupo parlamentario socialista tenemos la conciencia perfectamente tranquila porque nosotros en ningún momento nos hemos bajado de este tren nunca mejor dicho

ni tan siquiera en el propio ayuntamiento de galdakao como digo desde el grupo parlamentario socialista siempre hemos apostado por el tren como un medio de transporte sostenible accesible y sobre todo cómodo para los ciudadanos y ciudadanas sin duda alguna un proyecto

veintiuno otros que está promoviendo la propia autoridad la movilidad del transporte de bizkaia creo que facilitan que siga avanzando en cuanto a la modernización de sus infraestructuras pero nosotros creo que debemos de ser prudentes como partido que sustenta al gobierno y se lo ha dicho perfectamente también la señora

creo que está bien que prioricemos proyectos sobre todo proyectos estratégicos del calado que tiene este que hoy nos trae a este debate

se requiere de un desarrollo del propio proyecto en cuanto a su planificación y sobre todo se requiere una planificación en cuanto a las

algunos intervinientes que me han precedido y no dejo

no dejo de asombrarme porque en fin parece que estamos en una continua

ustedes no deja de ser una continua contradicción nos decía el señor becerra que estamos continuamente improvisando

que ya desde la época del lehendakari lópez está encima de la mesa de falta de voluntad sí tuviéramos falta de voluntad evidentemente hoy

que hemos firmado con el grupo eh bildu y que sienta las bases del desarrollo en cuanto a la planificación

la previsión presupuestaria que debiera de tener este proyecto hablan de lo que ha salido hoy en prensa y sin embargo

hemos acordado con el grupo parlamentario eh bildu parece que se fía mucho más de lo que dice la prensa que lo que décimos nosotros allá cada cual en quien deposita su confianza yo le invito a que lea la transacción y que vea lo que hemos acordado nos acusa de generar fractura social

primeramente las bases de este proyecto precisamente acordándolo con el ayuntamiento de galdakao e incluso haciendo alguna consulta a los

responsabilidad señor becerra yo entiendo que ustedes

cayendo en las prácticas más rancias de la política más vieja y más antigua no se rían yo entiendo que esto no les suele gustar

terminen mirando de reojo a sus objetivos en las próximas elecciones municipales

deben de ser bastante nuevos se les nota porque enseguida les

ustedes que son los reyes de la participación ustedes que son los reyes de la consulta pero parece que solo quieren consultar a sus bases para saber si

que ahora priorizan un proyecto sin tan siquiera caer en cuenta que quizá el ayuntamiento de galdakao o los ciudadanos de galdakao deban de decir algo al respecto o ya no les importa lo que dice la gente

que también pudiera ser resulta que ustedes aplican la máxima de la responsabilidad

y después resulta que sin ningún tipo de planificación sin ningún tipo de previsión presupuestaria llegan y dicen que este proyecto tiene que salir adelante sí o sí

de esta comunidad autónoma para que ese proyecto que es tan prioritario para ustedes se desarrolle me gustaría que me contestaran porque quizá ese ejercicio sí hubiera sido un ejercicio de responsabilidad

un ejercicio de buena gestión ustedes que se tienen por tan buenos gestores y tan responsables en fin yo creo que la apuesta por una infraestructura

de venir aquí a exigir no sé qué al gobierno

sí sienta verdaderamente unas bases sólidas para que este proyecto salga adelante y lo hace desde la responsabilidad haciendo un ejercicio de posibilismo solicitando a las instituciones responsables que realicen una adecuada planificación

y se realice también una planificación presupuestaria indispensable para que este proyecto sea una realidad a eso se le llama eficiencia en la gestión

no tiene ningún rubor sino todo lo contrario en acordar ese tipo de planificaciones con otros grupos parlamentarios porque eso precisamente lo hacen más

de responsabilidad y de sostenibilidad económica son los siguientes pasos que hay que dar y creo que además se complementa con un tercer punto al que yo particularmente también le doy mucho valor que es

hacer desde las instituciones para conseguir que todos los operadores se incorporen en un billete único que sin duda es un avance y es una firme apuesta

para que el día de mañana también tengamos un billete único a nivel de euskadi y les podemos decir que eso es un avance muy importante se lo puede decir la señora ugarte que le tocó gestionar y se lo podemos decir nosotros que también

gestionar esa cuestión y para finalizar a la señora llanos yo lamento que el proceder de este gobierno sea el que es y que seamos prudentes y que no vayamos a todas las localidades prometiendo una llegada de ave pero qué quiere que le diga nosotros somos así va en nuestro adn no es culpa nuestra no es nuestro estilo

no cumplimos procuramos hacer las cosas de la mejor manera posible aunque haya veces que evidentemente nos podamos equivocar o haya proyectos se dilaten en el tiempo como decía antes por una mera cuestión de disponibilidad presupuestaria una disponibilidad presupuestaria que lamentablemente a ustedes también se les ha olvidado en cuanto a este proyecto que hoy nos traen aquí porque sí quiero recordar que no existe

cuando menos lo suficientemente amplia en las enmiendas que ustedes incorporaron al presupuesto de esta comunidad autónoma para que este proyecto a la mayor brevedad posible por tanto siendo conscientes de nuestras limitaciones

este proyecto haciéndolo desde la responsabilidad desde una planificación adecuada y como es debido por tanto yo

gobierno y sobre todo apelo a una enmienda transaccional

señor becerra he de confesarle que después de seguir atentamente la sustanciación de su interpelación sobre este tema el pasado día veintisiete de abril pensaba que no iba a presentar moción al respecto

usted mismo mencionó ese día varios de los conceptos claves en este tema usted mismo decía en su intervención

que está elaborando el plan estratégico dos mil dieciocho dos mil veintiocho

e integradora cuánto dinero se necesita para hacer las infraestructuras y cómo se tienen que organizar como clasificar y priorizar esas obras y cuándo empezaran y cuando finalizarán también se le dijo que en el mes de julio es decir en poco más de un mes

que igual no presentaba la moción no obstante y a pesar de todo ello y legítimo por supuesto usted ha presentado esta moción solicitando que se planifique sin esa visión integral la línea cinco y en mi discurso pues me van a servir muchas de las manifestaciones expuestas

a la señora llanos en el debate sobre la línea cuatro la señora consejera en su respuesta a la interpelación anteriormente mencionada

con total claridad y transparencia cuál es la situación concreta actual respecto a la línea

los estudios informativos aprobados en los dos tramos proyectos constructivos también finalizados

entre el hospital y usansolo para analizar cuál es la mejor solución de ahí

en línea con lo dispuesto en la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis de aprobación del estudio informativo del tramo galdakao centro hospital también le decía cuál es el presupuesto estimado de esta obra alrededor de doscientos setenta millónes de euros

que asciende a treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete a más de trescientos setenta y cuatro millónes de euros

sin contar la línea tres luego dice usted que no hay compromiso con el transporte público sailburuak

la llegada de la alta velocidad a bilbao la construcción de la variante sur ferroviaria la conexión de metro con el campus de leioa

en enero del próximo año y creo que era la señora llanos la que decía que este gobierno no tenía

como ven muchos proyectos compromisos con bizkaia y también con gipuzkoa y araba proyectos proyectos señor becerra no anuncios de obras para darse publicidad

de la ciudadanía vasca y que requieren reflexión hay que analizar cada uno de los proyectos y evaluar lo que se denomina coste beneficio sin olvidar la situación financiera antes mencionada

con la señora consejera que cuando hablamos de una línea de metro no debemos considerarla como una isla sino que por el contrario forma parte de un sistema completo e integrado de transporte nosotros entendemos nosotras y nosotros entendemos que el conjunto de los sistemas del trasporte debe funcionar de forma integrada coordinada y sin duplicidades donde la red ferroviaria constituya el eje del transporte público

el transporte público tiene que tener una visión integral y multimodal evitando duplicidades garraio sistemak integratzearen alde egiten dugu horretarako bilatzen dugu

giza baliabideak efizienteak izatea decía usted también

que cualquier responsable político en este país tiene que ser claro decía no prometer lo que no puede cumplir aunque sea impopular y honesto para que diga la verdad aunque no quede bien yo le añadiría algo más yo creo que además de claro y honesto tiene que ser responsable y actuar con seriedad

decía de dar la palabra mencionaba usted el dar la pablara bueno yo creo que dar la palabra los partidos políticos la damos cada cuatro años y se traduce en los programas electorales a los que también aludía la señora

de esto también si quiere luego podemos hablar el programa de gobierno de la presente legislatura establece el compromiso de dar continuidad a los estudios necesarios

se lo decía la señora consejera este compromiso es lo que se está haciendo y lo vuelvo a decir le digo cuál es la situación actual de los proyectos por lo tanto

además de responsables serios y rigurosos la señora llanos también aludía al programa electoral claro tanto insistir al programa electoral uno tiene la tentación de ir a ver qué dice el partido popular en su programa electoral

decía abordaremos una apuesta cierta por las líneas cuatro y cinco del metro de bilbao luego usted suele hablar de la terminología empleada por el partido nacionalista vasco

decía que administraremos con eficiencia los recursos públicos máxime teniendo en cuenta que la crisis económica en euskadi aún no se ha dejado atrás

presupuestaria las obras que están en fase de diseño esto decía el partido popular y lógicamente esto lo podemos suscribir tranquilamente

qué es lo que dicen otros y luego cómo actúan en consecuencia no voy a entrar en el tema de incumplimientos de plazos porque creo que de esto ya hemos hablado en más ocasiones

me voy a ir a la política de inversión e infraestructuras creemos que hay que hacerla planificando bien reflexionando realizando el análisis coste beneficio y preparando todos los proyectos quizá la dinámica de podemos es otra yo no sé si porque no tiene experiencia en gobernar parece que les molesta que se hagan proyectos para que en el momento necesario puedan llevarse a cabo y no haya que empezar a revisarlos un proyecto de esta envergadura lleva

de impacto ambiental y por lo tanto la administración lo que tiene que hacer es tener proyectos para cuando se presenta la oportunidad bien por oportunidad política bien por oportunidad económica puedan ejecutarlos y llevarlos a cabo si no tienen los proyectos y en ese momento se ponen a elaborar los proyectos pues

una vez finalizada la planificación y realizado el análisis coste beneficio dentro de la autoridad de la movilidad de bizkaia se tomará la decisión oportuna y se tomará como decía

con todos los proyectos finalizados y con toda la seriedad y rigor del mundo y no tenga dudas señor becerra de que será una solución satisfactoria

a raíz de las palabras del señor diputado general de bizkaia y como sabía que esto iba a pasar

que me pasasen la intervención del señor rementeria para que no haya lugar a dudas le voy a leer literalmente lo que dijo el señor

unai rementeria el ferrocarril es la clave del transporte moderno

me gustaría unir la red de metro con galdakao y el hospital de usansolo y hacerlo de forma eficiente aprovechando las infraestructuras que hay combinando y empleando la red

con las mejoras y nuevos tramos necesarios para dar un servicio óptimo al ciudadano

no voy a seguir pero con esto creo que queda claro cuál es el posicionamiento de la diputación foral de bizkaia que coincide con lo también manifestado con la consejera el día tres de marzo en esta cámara donde decía que la red ferroviaria constituye el eje de dicho transporte público

todos los modos de transporte para buscar la eficiencia para dar el mejor servicio posible evitar duplicidades y buscar la mejora del servicio a la ciudadanía tenemos que centrarnos en dar un buen servicio

a esas necesidades de todas las personas por lo tanto creo que

la voluntad está clara es solucionar los problemas de movilidad de galdakao de los vecinos y vecinas de galdakao y su entorno y agradecer

a llegar a un acuerdo donde se ha incorporado también como decía el señor

el punto tercero de apoyar al gobierno y a la diputación para que consiga la implantación completa ya se está

y superando las dificultades existentes actualmente entendemos

racionalizar y priorizar los recurso gobernar es establecer prioridades señor becerra y en esta línea y antes de finalizar sí quisiera realizar una pregunta

en este segundo turno de intervención que es muy clara también me imagino su respuesta pero bueno sin demagogia señor becerra usted qué priorizaría la línea cuatro de rekalde

ustedes en sus intervenciones sobre la planificación estratégica

existía esta planificación estratégica y que se iba a presentar en este mes

pero precisamente si presentamos esta moción fue por los temores y las dudas que se nos generaban respecto del contenido que iba a tener esa planificación estratégica y hoy tenemos que decir que

hemos acertado lo que ha habido aquí es una ocultación clara de las intenciones que tiene ahora mismo la administración en bizkaia sobre la línea cinco del metro y es la de

estaba planteado en su momento no hacer ese proyecto y hacer otra cosa qué otra cosa habrá que verlo

no había tenido la oportunidad de ver esta transacción que ha firmado el grupo eh bildu con el gobierno

porque se la podían haber ustedes evitado quiero decir tienen derecho a defender su postura pero esto esta enmienda esta transacción es una transacción

de blanqueo a la falta de voluntad que lleva teniendo el gobierno después de doce años porque básicamente es una especie de transacción de que sigan trabajando que es lo que no han hecho hasta ahora en esta transacción

que no tiene plazos una vez más que no tiene presupuesto una vez más que no se sabe quién va a pagar una vez más si es una alternativa de trazado basada en el ferrocarril la diputación foral de bizkaia no tiene competencias todo el coste le va a recaer al gobierno vasco cómo se va a pagar ya sabemos

pero no solamente es una transacción de blanqueo a la falta de voluntad es una transacción de blanqueo a la falta de compromiso

ni siquiera el propio gobierno ha hablado de utilizar las alternativas más baratas o de que los recursos son finitos es curioso que lo haya tenido que decir eh bildu ayer dijo el señor rementeria

ahora sabemos decir que sí porque podemos pagarlo y es bueno para bizkaia

se refiere al subfluvial de lamiako se refiere al transporte privado a eso se refiere el señor rementeria hay dinero pero lo hay para el transporte privado y ustedes con esta transacción están blanqueando la intención clara de la diputación de bizkaia de apostar una vez más por el transporte privado

es una pena yo entiendo que ustedes quieran meter el billete único en esta cuestión y además es una propuesta muy defendible pero si no hay transporte público el billete único no sirve de nada los habitantes de galdakao dónde van a meter el billete único en qué canceladora van a meter el billete

en el fondo esta transacción es un blanqueo a la tomadura es una tomadura de pelo y un blanqueo de las intenciones oscuras que ha tenido el gobierno

de basauri respecto a la gente de aperribai

lugares que son de voto socialista vaya usted ahora y dígales cuáles son las bases de este acuerdo y explíquenles

con la línea de ferrocarril no van a tener servicio no van a tener servicio vaya usted a explicarle a la gente de etxebarri

por la lanzadera del metro que ahora les van a decir que ni lanzadera ni metro ni una cosa ni la otra y vayan ustedes todos estos grupos

que una vez más sus prioridades se van retrasando los habitantes de galdakao claro que ya se han pronunciado cuarenta mil firmas recogieron cuarenta mil firmas

con la línea de metro esto es una traición en toda regla a todos los habitantes de la comarca

y además tengo que decir que estos planes no son nuevos la señora tapia ya dijo en noviembre de dos mil diecisiete que estaban estudiando otras alternativas lo hizo en la comparecencia de presupuestos

se han seguido haciendo todos los proyectos constructivos de la línea cinco de metro a sabiendas de que se están estudiando otras alternativas

de euros gastados en balde cuando ya sabían que estaban manejando otras alternativas

nuestra prioridad nuestra respuesta línea cuatro y cinco de metro en lugar

inútil cara e innecesaria eskerrik asko becerra jauna

la verdad es que en esta cámara uno nunca deja de sorprenderse

más capacidad de sorpresa no cabe pues sí cabe sí cabe señora ugarte

de verdad porque si no vamos

porque el señor zorrilla le puede dar las gracias ha defendido usted

donde va a parar vamos y dice usted mire

eh bildu siempre siempre ha estado en contra de la línea cinco del metro y va a aplaudir con las orejas cuando la línea cinco del metro no sea porque visto lo visto no se va a hacer

de que hay que actuar con responsabilidad y que los recursos no son finitos mire

como le parezca pertinente pero también hay un dicho que dice que uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios y créame

los miembros de eh bildu lo comparten así pero en más de una iniciativa el partido nacionalista vasco va a sacar estas palabras

y luego con relación a si eso no es una alternativa cuando le conteste el partido nacionalista vasco y bueno y decía usted que apostar por una no no oiga mire está claro que el dinero como usted bien ha dicho mire es de las cosas que comparto con usted los recursos son finitos y como son finitos hay que priorizar

ya no llega para la línea cinco y la línea cuatro y eso es así ustedes no poniendo la maquinaría para que haya línea cuatro y línea cinco pues van a permitir que se haga la supersur ya

es bien sencillo el partido socialista vasco

al portavoz de nuestro grupo parlamentario al señor sémper

nueve años de prudencia decía que no se puede ir con promesas

señor arriola un proyecto de línea cinco de metro un proyecto eso qué era los proyectos no son promesas

y que llevan unos tiempos claro y

de estudios y de reflexión que de verdad reflexionamos más

en el ayuntamiento de galdakao y hablaba usted de escuchar al ayuntamiento de galdakao y a los ciudadanos que los dos han hablado

y el ayuntamiento de galdakao ha presentado una moción que se debate si no me equivoco yo esta semana

la línea cinco no ese proyecto que ahora se han sacado ustedes de la manga aprovechando la línea

que eso sí que lo tenía que pagar solo el gobierno vasco pero no eso no ahí vamos a ver si hacemos esto para que

cinco del metro de bilbao y al partido nacionalista vasco le digo lo mismo que no hay que coordinar y que no hay que duplicar y el señor rementeria decía ayer eso todo nuevo no se puede hacer que esto no es nuevo que es que esto no es nuevo

estas son la línea cinco y eusko trenbideak sí sí van paralelos pero es que oiga lo que aparece aquí en el papel no tiene nada que ver con la realidad

para en ariz de aperribai

y si se tienen que comunicar o tienen que utilizar el transporte público a través de un autobús o tienen que utilizar el coche

también un poquito lejos de bengoetxe de aperribai del centro del pueblo verdad

un poquito lejos también y usansolo bueno está un poquito más cerca del municipio pero bueno también tiene sus problemas que no que son dos cosas diferentes que no da el mismo servicio que no se trata de ir corriendo de un lado para otro que la línea cinco

ahora que ustedes han decidido en esta enmienda de digo pero no digo

a lo que diga la autoridad de la movilidad a las alternativas al estudio y bueno si eso luego lo de la tarjeta única que como le ha dicho el señor becerra

en la cartera les quedará muy bien llevarla pero vamos si luego no la pueden utilizar

de poco les va a servir amaitu mesedez sí voy acabando y no se trata de claro que se trata de y ustedes qué prefieren
línea cuatro o línea bost lo ha dicho el señor becerra las dos y nosotros queremos el subfluvial de lamiako claro

más prioritarias y cuáles son menos y a nosotros nos parece que la línea cuatro y la línea cinco son prioritarias pero es que nos parece que son prioritarias desde hace

mucho tiempo y si ya se hubieran realizado en plazo cuando se prometió por parte del gobierno socialista pero que luego

ahí se quedó pues ahora eso ya estaría finalizado y podríamos estar hablando de infraestructuras que nosotros podemos considerar necesarias y pertinentes que también llevan retraso como decía

pero que ahora van a hacer elegir a la ciudadanía cuando una de debiera haber hecho ya

o por lo menos yo no dejo de sorprenderme que veo a los señores de podemos que lo mismo se oponen al tren de alta velocidad

lo mismo se oponen al túnel de serantes porque afecta gravemente

urbanísticas acaso este proyecto no tiene afecciones urbanísticas

bola usted es adivino y usted sabe lo que va a pasar antes que los demás

aquí cada cual tiene lo suyo igual desconocemos una faceta que usted tiene y que todavía no hemos

lo mismo solicitan consultas por lo más peregrino que les importa un bledo lo que pueda decir tan siquiera el ayuntamiento de galdakao o los propios ciudadanos les importa un pimiento ustedes modulan todo a su antojo ustedes modulan siempre todo a su antojo oiga o lo mismo consideran este proyecto algo absolutamente irrenunciable algo absolutamente prioritario

no meten ni un solo euro en sus enmiendas al presupuesto que ni tan siquiera lo nombran en su programa de autonómicas pues cuáles son sus prioridades

una prioridad para ustedes la línea cinco de metro a qué están jugando a qué están jugando señor becerra le veo excesivamente preocupado por los caladeros de votos del partido socialista

infinitamente mayor que el suyo ustedes además de ser los reyes de la demagogia se creen que son magos ilusionistas y que de repente van a sacar de la chistera un conejo y por arte de

por su intervención aquí todos los ciudadanos van a tener una línea de metro a su disposición y no es así señor becerra es así la política no es esto la política no es esto la política también es responsabilidad es planificación es sostenibilidad económica eso es la política

a sitios intentando rascar cuatro votos a otros partidos políticos que es a lo que se están acostumbrando ustedes y así les va también y así les va también hablan de prevención por parte de este gobierno

yo creo que políticamente son bastante hipocondriacos porque en fin yo creo que este gobierno lo que está haciendo es dar los pasos que debe ni más ni menos habla de blanqueo para usted es un blanqueo sentar las bases de la planificación para que este proyecto sea una realidad eso es blanqueo eso es eludir la responsabilidad como gobierno

yo creo que los proyectos salen acordando salen pactando presupuestos que es un ejercicio que deben de hacer ustedes también

diciendo que no a todo para que después les saquemos los colores en cualquier debate porque dentro de sus enmiendas presupuestarias no tienen

de lo que ustedes consideran prioritario tan prioritario es algo que no cuenta

un solo euro en sus enmiendas a los presupuestos tan prioritario es pero si no aparecen ni en su programa de gobierno pero de qué están hablando señor becerra de qué nos están hablando cuando ni tan siquiera hacen mención a ese proyecto en su de gobierno si tan prioritario es por qué lo esconden o es que van descubriendo cosas a medida que pasa el tiempo se van sacando cosas de la chistera como le decía en fin señora

entrar en la cuestión competencial que creo que la señora ugarte se lo ha explicado perfectamente si ha querido lo ha entendido y si no

pues somos prudentes qué quiere que le diga nosotros no tenemos la habilidad del señor

en todos los pueblos por lo que pisa igual tiene que venir aquí a explicarnos cómo lo va a hacer

y que nos permita que todos los pueblos de euskadi tenga una parada de metro en su localidad pues igual lo descubrimos no sé quizás tenga que venir

en fin estudio informativo o proyecto porque que yo sepa el señor arriola lo que tenía era un estudio informativo no un proyecto y creo me imagino que sabrá distinguirlo perfectamente además por lo cual no nos hable de proyecto cuando lo que tenía era un estudio informativo son cosas totalmente distintas no tiene absolutamente nada que ver

y le digo exactamente lo mismo tan prioritario es que ustedes no metieron tan siquiera tan siquiera una partida presupuestaria lo suficientemente amplia para desarrollar absolutamente nada mire aquí

saben ustedes lo que han presentado tangiblemente y con un mínimo de seriedad para que este proyecto sea una realidad mire yo también se enseñar papeles esto
un papel en blanco absolutamente nada a ver si empiezan ya hacer algo gracias eskerrik asko andueza jauna

señora llanos usted realmente cree que si se pudiera el gobierno vasco y la diputación no afrontaría estos proyectos hemos hablado de los proyectos en los que se está trabajando

muchos más pero hay que actuar como decía con responsabilidad rigor y seriedad además en la línea de lo que ayer manifestaban varios de sus dirigentes en madrid que reconocían que el partido nacionalista vasco

y también le leía antes su programa electoral lo que decía se corresponde con lo que se está haciendo y es de un partido responsable administrar con eficiencia

aún no se ha dejado atrás y revisar bajo criterios de eficacia presupuestaria las obras que estén en fase de diseño

decían ustedes en el programa electoral con el que se presentaron que es responsable

iniciativas que aquí plantean también decirle que usted se empecina en la infraestructura se lo decía el otro día la señora

no es clave la infraestructura o el soporte físico para prestar el servicio

que ese servicio sea de calidad y sea eficiente hoy mismo

a las necesidades de movilidad de la ciudadanía señor becerra nos decía falta de compromiso del gobierno vasco y diputación con el transporte público queda muy bien pero

línea tres doscientos ochenta millónes de euros más otras actuaciones en otros territorios más déficit de explotación asociado más ciento cuarenta millónes del departamento de transportes movilidad y cohesión territorial de este ejercicio dos mil dieciocho donde cobra especial protagonismo bizkaibus y el consorcio y las deudas y los gastos que tiene que hacer frente en consorcio de transportes de bizkaia

no se corresponde esa falta de compromiso con los hechos con las palabras puede decir lo que quiera pero los hechos dicen otra cosa y respecto a la pregunta pues ya sabía su respuesta era previsible señor becerra pura demagogia en su línea le preguntaba eso porque a pesar de ser un proyecto como usted decía anunciado o presentado en dos mil seis

y como decía el señor andueza en el programa electoral de elkarrekin podemos no aparece ninguna referencia expresa ni a la línea cuatro

su programa muy extenso con ochocientos noventa y ocho medidas dedicaba nueve medidas a la movilidad sostenible e infraestructura previamente hace una reflexión

si se fundamenta en el transporte no motorizado todas las demás propuestas

inter modales para lanzar metro bicicleta autobús y tranvía son complementarias a esta idea central

inicial pero analizando las nueve medidas relativas a movilidad sostenible e infraestructuras de las cuales cuatro cuatro eran noes cuatro eran noes no a la ampliación del puerto de pasaia no a la ampliación de los aeropuertos vascos

de las otras cinco que restan ninguna hace referencia expresa a la línea cinco de metro tampoco a la cuatro a pesar de que como decía usted es un proyecto anunciado allá por el dos mil seis ha tenido tiempo

de sus intenciones señor becerra claridad y honestidad señor becerra

andueza como esto se hace con recursos económicos hay que mirar qué enmiendas al presupuesto del gobierno han presentado sobre este tema

no hay ninguna enmienda presentada por elkarrekin podemos para poner en marcha la línea cinco del metro hablaba usted en su primera intervención de que se juega con las expectativas y el cabreo de la gente en algunos casos hasta inducidos

y decía que nosotros queremos darle nuestra palabra a la ciudadanía de galdakao y su entorno

enmiendas al presupuesto ni una enmienda a ustedes les gusta mucho coger el testigo de la pancarta lo han intentado con los pensionistas primero plantean aquí

esa subida a madrid y luego plantean los mil ochenta euros lo han planteado con la naval lo han planteado con muchas empresas lo han planteado con la línea cuatro de rekalde ahora con la línea cinco

no sé si buscando caladeros de votos como decía el señor andueza pero claros y honestos

y nada serios ni rigurosos y termino repitiendo lo manifestado en mi primer turno de intervención

actuarán con responsabilidad rigor y seriedad para dar satisfacción a las necesidades de movilidad de los vecinos y vecinas de galdakao y su entorno no tenga ninguna duda besterik gabe eskerrik asko

señores consejeros señorías nuevamente traemos a esta cámara un convenio firmado por ura agencia vasca del agua en este caso con el ayuntamiento de vitoria convenio para la ejecución del plan contra inundaciones en vitoria

convenio uno más no cumplido convenio en el que ura se comprometía con veintiuno

a ejecutar las acciones que se contemplan en dicho plan para el periodo dos mil trece dos mil veinte

hay que recordar que la primera fase y las primeras obras para evitar inundaciones se ejecutaron en dos mil cinco entre eskalmendi y gamarra y que frenaron las afecciones a los polígonos industriales de estas zonas obras financiadas por el gobierno de españa estas obras

casi todos los años y en algunas ocasiones incluso varias veces sufrían inundaciones del éxito de estas actuaciones y de la necesidad de seguir actuando vino este convenio este año

llovió intensamente en vitoria ello provocó nuevamente

y aislamiento de poblaciones como abetxuko asteguieta villodas durana etcétera provocando daños difíciles de cuantificar

una primera valoración y dice así la nefasta gestión

han ocasionado cuantiosos perdidas en cultivos abonos y tierras agrícolas

los daños totales hay que esperar a evaluar según cómo van produciéndose el cultivo y el crecimiento de estos cultivos

a la cual pertenecen pueblos de la ribera del zadorra desde abetxuko hasta nanclares de la oca han presentado una reclamación

en la que exponen lo siguiente la inundación pudo ser evitada pero no se hizo

que no permiten otras actuaciones más congruentes con la defensa contra las inundaciones

la limpieza del cauce del zadorra que lleva años invadido por arbustos

y les voy a enseñar alguna foto por ejemplo esta es una foto invadido el cauce esta

años en esa situación como les decía muchas iniciativas en esta cámara presentadas para la limpieza de los ríos nunca

si los ríos hubiesen estado limpios el cauce del zadorra limpio desde luego

avenidas hubiesen sido muchísimo más reducidas de forma reiterada se ha solicitado a ura la limpieza del zadorra y ha hecho caso omiso

pero por la rotura de una mota en gobeo porque no han autorizado nunca reforzar esa mota porque ura lo deniega permanentemente la suciedad y abandono de los ojos de los puentes que cruzan el zadorra desde abetxuko hasta tres puentes es notoria

ni caso la limpieza del puente mamario en margarita es inexistente desde hace años

agrícolas ni caso oídos sordos durante los años dos mil trece dos mil dieciséis y dos mil diecisiete este suceso ha causado graves daños a los cultivos

volverá a suceder la oposición a las

el zadorra y saben que el descenso de demanda de unos veinte hectómetros cúbicos anuales causa por menos uso por la industria permite rebajar la curva y tener un colchón para episodios como el ocurrido tanto la diputación foral de álava por boca de su presidente el señor ramiro gonzález

instaban a ura a acometer cuanto antes su parte del plan de prevención contra inundaciones porque efectivamente el ayuntamiento de vitoria hace tres años

y ura no ha hecho absolutamente nada en estos tres años dice que lo va a hacer pero desde luego hasta el momento nada

sabe buscar excusas y seguirán las inundaciones nos dicen que este plan está recogido en el real decreto del plan hidrológico y que se realiza una priorización

de las actuaciones y que hay que valorar los riesgos por persona bienes afectados así como el coste beneficio de las obras qué casualidad

solo lo citan cuando hablamos de las infraestructuras hidráulicas pendientes en álava solo lo utilizan nada de esto dicen por ejemplo mañana se va a debatir un plan de vivienda en su departamento en esta cámara ni más ni menos que hablamos

con chiringuito incluido claro solo con el diez por ciento de esto se pueden acometer las obras pendientes de álava cuál es la apuesta cuál es la voluntad

va a ser cierto lo que el señor ángel resa decía en su columna el tragaluz referente a este asunto y decía lo siguiente

pero temo para mí que estas obras tan necesarias resultan poco vistosas y figuran en el escaparate como un calzador vamos

y cuesta traducirlas en votos contantes y sonantes y a salvo de las riadas electorales vale díganme suspicaz

porque señorías qué nos dice el gobierno qué nos dice el señor consejero

sin desatender de forma razonable las necesidades que pueden ser más perentorias

porque señorías las avenidas las inundaciones en álava en la vertiente mediterránea solo afectan a dos mil personas y en vitoria afectan a quinientos y que en la zona del cadagua y del nervión afectan a ciento cuarenta mil personas esto nos dice el señor consejero va a ser cierto lo que dice el señor resa en su columna señor consejero que estas obras resultan poco vistosas cuestan mucho resultan poco vendibles y cuesta traducirlas en votos

señorías nosotros desde el grupo popular a lo nuestro y reiteraremos en esta tribuna cuantas veces sean necesarias los incumplimientos del gobierno y reivindicar las inversiones comprometidas y no ejecutadas por eso presentamos la

proposición no de ley en esta cámara proposición a la que se han presentado enmiendas y que hemos llegado a una enmienda de transacción

unos límites unas líneas rojas que no hemos podido aceptar yo creo que hay puntos de esta enmienda de transacción que pueden aprobarlos y votarlos a favor entiendo que tienen por lo menos algún porcentaje de voluntad

estas obras nosotros décimos en la enmienda de transacción el parlamento vasco insta al gobierno vasco a acometer con urgencia las actuaciones pendientes del acuerdo marco en colaboración firmado en octubre de dos mil doce

para la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones en el término municipal de vitoria gasteiz

dote de disponibilidad económica las partidas que soportan la inversión de las actuaciones de gestión y prevención de defensa contra inundaciones previstas en el acuerdo marco de colaboración firmada en octubre de dos mil doce entre el ayuntamiento de vitoria gasteiz y la agencia vasca del agua el parlamento vasco décimos en el punto tres insta al ayuntamiento de vitoria gasteiz y a la diputación foral de álava a acometer con urgencia la actualización y ejecución del proyecto de la fase tercera

con la colaboración del gobierno vasco en la redacción y tramitación del proyecto a través de la agencia vasca y en el punto cuatro instamos al gobierno vasco a activar los trámites necesarios para adelantar las actuaciones previstas en el acuerdo marco firmado entre el ayuntamiento de vitoria gasteiz y la agencia vasca del agua ura

intensificando la colaboración con el ayuntamiento la definición final del proyecto

corresponde a este ente local según el citado acuerdo señorías nosotros queremos insistir en la necesidad de aportar o de afrontar con urgencia estas obras les hemos explicado los daños que reiteradamente causan

se han explicado muchas veces en esta cámara el señor consejero compareció hace dos meses aproximadamente señorías es cuestión de voluntad es cuestión de priorizar y esto es urgente es urgente por lo tanto nosotros apelamos a la sensibilidad de este gobierno sí es que la tiene este departamento para hacer todos los esfuerzos necesarios y atender también esa urgencia que se pedía desde la diputación foral de álava y el ayuntamiento de vitoria creo que son unos daños reiterados

que están sufriendo las mismas personas y que están hartas muy hartas muy aburridas de sufrir estos daños

de que se van a ejecutar y estamos en el dos mil dieciocho y esto tiene visos de dilatarse diez años

por eso apelo a los grupos que apoyan al gobierno a que apoyen
esta enmienda de transacción nada más muchas gracias eskerrik asko lópez de ocariz anderea

muchas gracias señora presidenta egun on denoi o al menos a la mitad de la cámara porque la otra mitad ha decidido que no le interesa este punto

debatir en torno a una iniciativa del grupo popular referente al plan anti inundaciones para gasteiz no es la primera vez que las instituciones vascas y alavesas

a su paso por el término municipal de vitoria gasteiz llevan años encima de la mesa pero necesitan de presupuesto programas de ejecución y en definitiva voluntad política y apuesta institucional para que sean llevados a cabo

de vitoria gasteiz finalizó en dos mil cuatro pero quedan las fases dos tres y cuatro dos de ellas incluidas

entre la agencia vasca del agua y el ayuntamiento de vitoria gasteiz para elkarrekin podemos es importante tal y como apuntan colectivos

en el citado acuerdo marco firmado en su día entre la agencia vasca del agua ura y el ayuntamiento de vitoria gasteiz para cumplir un triple objetivo

contribuir a la restauración ecológica de ríos y de sus riberas y acondicionar para el uso público un espacio verde

a los recorridos peatonales y ciclistas que forman parte del anillo verde de la ciudad como digo en el acuerdo marco se incluían las fases dos y cuatro además del plan de mejora hidrológica e hidráulica de los ríos eskibel

el plan de mejora de los ríos del sur de vitoria poniendo especial atención al proyecto de obras de prevención

en las denominadas graveras de lasarte el acuerdo firmado por el señor

la fase tres ya que la misma necesita de un acuerdo interinstitucional contando con la diputación foral de álava y un convenio de colaboración que tampoco conocemos

algo que nos parece muy obvio y que ya se lo hemos dicho en varias ocasiones cuando se firman acuerdos institucionales y convenios estos son para cumplirlos y para cumplirlos

acordado y digo parece porque el gobierno vasco no está cumpliendo en el caso de las obras para prevenir inundaciones en la ciudad de vitoria gasteiz y no se está cumpliendo porque ura no pone el dinero que comprometió y echar balones fuera

la responsabilidades que se acordaron entendemos que es una falta de responsabilidad es evidente que el plan contra inundaciones apenas se ha cumplido en álava

desde eskalmendi hasta gobeo pero en este tiempo apenas se han invertido cinco millónes de euros entre el periodo de dos mil doce a dos mil veinte tal y como aseguró

por nuestro grupo parlamentario y teniendo en cuenta que de estos cinco millónes la mitad

para el paso del tranvía menos de un veinticinco por ciento de lo acordado en un setenta y cinco por ciento del tiempo y del plazo estimado habiendo realizado obras menores pero lo principal que es el cauce de derivación del río zadorra falta por hacer en dos mil dieciocho

de un coste total de dos coma siete millónes de euros esto muestra en parte la falta de compromiso de los gobiernos vascos en estos años y con esta situación encima de la mesa el pasado mes de abril

y provocar inundaciones en distintos puntos del territorio afectando directamente al día a día y a la vida

cerca y alrededor de la cuenca del mismo siguiendo con el acuerdo marco la fase dos que comprende las obras de defensa contra inundaciones del río zadorra

mayor no tiene asegurado el presupuesto de cara a dos mil diecinueve y lo mismo pasa

aunque el gobierno se ha comprometido a tenerlo pero para tenerlo

hay que tener un presupuesto y entendemos que entonces no se puede prometer algo que sabemos que no se va a hacer hay que tener en cuenta

sobre estas obras no es exactamente lo mismo por ello en la enmienda que presentábamos instábamos al gobierno vasco a finalizar las obras de la fase dos dentro del plazo establecido

y el ayuntamiento de vitoria gasteiz destinando la dotación presupuestaria necesaria para ello así como acordar

y un plan de financiación para las obras de la fase tres a través del correspondiente convenio de colaboración supimos en febrero que las actuaciones de la fase cuatro es muy probable que se demoren hasta dos mil veintisiete o sea o eso se contempla desde el departamento de medio ambiente hasta el dos mil veintisiete mientras que el ayuntamiento vende una posibilidad de obtención de ayudas europeas

las actuaciones a dos mil diecinueve no son los plazos que se acordaron ni siquiera sabemos de dónde va a salir el dinero para pagar la fase cuatro

aún no sabemos ni siquiera aunque no lo sepamos no hay un convenio firmado en el caso de las obras de prevención de inundaciones en los ríos del sur

acelerar las actuaciones para llevar a cabo las obras que no solo evitan inundaciones sino que además

uno millón de euros más de los que debería para depurar aguas fluviales que terminan en la depuradora de crispijana porque no se hacen las obras que permitirían evitar que entre en el sistema de alcantarillado de la ciudad de hecho los estudios ya están hechos hay estudios de contaminación del suelo y sabemos que está contaminado este ejemplo permite ver con claridad que las obras para mejorar el medio ambiente son rentables los trabajos para evitar las inundaciones en los ríos del sur de vitoria se podrían amortizar en menos de siete años es una inversión

por qué entonces no son prioritarias para el gobierno y para las demás instituciones eso es lo que nos preguntamos exigimos al gobierno vasco un compromiso claro y firme para financiar las obras de prevención de inundaciones en el zadorra y en los ríos del sur de vitoria gasteiz

previstos en el acuerdo marco que son para el dos mil veinte

que hemos firmado una enmienda de transacción que bien ha explicado la señora lópez de ocariz insta a cometer actualizar y ejecutar con urgencia las medidas y actuaciones pendientes

y a la coordinación interinstitucional para la financiación y el adelanto de las actuaciones previstas

no se sumen a este acuerdo ya que para elkarrekin podemos no es posible hablar de seguir continuar intentar o ver si es posible sino de ejecutar acometer y tomar medidas con urgencia hay que cumplir con los acuerdos y actuar

y no seguir mirando hacia otro lado mila esker eskerrik asko garcía andrea

suficientemente explicadas y no voy a volver a repetirlas pero que en cualquier caso creo que es absolutamente indiscutible el diagnóstico de la situación que se hace la situación de los ríos del sur en la ciudad de vitoria gasteiz es una situación preocupante y nos preocupa todavía más políticamente porque hubo acuerdo en dos mil doce para llevar a cabo las necesarias obras que tampoco se está poniendo en marcha en estos momentos el embocinamiento de los ríos del sur en el alcantarillado municipal

los ríos del sur aportan un caudal anual de cinco hectómetros cúbicos es decir de cinco millónes de metros cúbicos el equivalente a dos mil piscinas olímpicas y son millónes de metros cúbicos de agua limpia que se contaminan precisamente al mezclarse con las aguas sucias o contaminadas que están en el sistema de saneamiento y esto es un terrible

pero sobre todo acaba siendo también una sobrecarga absolutamente innecesaria diaria

pero además lo que ocurre en los momentos de avenida y la verdad es que estamos viviendo situaciones de este tipo este año

la depuradora se desborda y los vertidos incontrolados acaban contaminando al zadorra pensemos además

es el efecto y la contaminación que están asumiendo todas las personas que viven aguas abajo

y por ejemplo y creo que esto es un dato muy significativo que hace que todavía sean más urgente el planteamiento de esta obra

el mes de abril que todos sabemos cómo este que ha sido muy lluvioso con una elevada pluviometría han entrado al sistema de alcantarillado seis millónes cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos ochenta y tres metros cúbicos

se han tenido que bypasear directamente al río casi la mitad

no ha sido tratado por la depuradora y solo se ha podido tratar en la depuradora debido como esta dimensionada tres millónes cuatrocientos ochenta y ocho mil doscientos sesenta y ocho metros cúbicos es decir que vitoria gasteiz en abril

y esto es un dato que creo que no nos podemos permitir en absoluto además además a esto se une que es una amenaza constante en forma de inundaciones para los barrios del sur de la ciudad

la tiene la agencia vasca del agua ura que no ha cumplido además este acuerdo firmado en el dos mil doce que incluía precisamente en su punto tercero las obras de prevención de las inundaciones y en estos años no se ha hecho nada

que en febrero dio el consejero iñaki arriola asegurando además que se posponía aún más estas obras hasta el decenio

y además que afectarían también a todos los vecinos de la zona sur y a todas las personas que viven aguas abajo y además tenemos unos datos

son razones para que ura acometa cuanto antes esta obra porque tenemos que por un lado hacer ver solucionaría el principal punto negro de los ríos de vitoria gasteiz

pero además tenemos y podemos plantear que se produciría un importante ahorro un importante ahorro la cuestión y los datos que tenemos sobre la mesa son los siguientes la aportación

la depuradora de crispijana gasta uno millón de euros para tratar

si lo que necesitamos de obra son seis millónes de euros para iniciar las fases

eso quiere decir que amvisa en seis millónes tendría perfectamente amortizado el coste de esta obra

con todo grupo que traiga aquí la necesidad y la defensa de hacer estas obras con todo vamos a estar de acuerdo pero nos parece que también se pueden hacer proposiciones euskal herria bildu hizo esa propuesta primero en amvisa y posteriormente también se adoptó en el ayuntamiento de vitoria gasteiz y es

el problema sea una cuestión de financiación que la propia sociedad amvisa puede adelantar el dinero para hacer la obra teniendo el acuerdo que posteriormente ura la responsable de hacerlo

es un acuerdo fácil es un acuerdo sencillo y permitiría precisamente desbloquear lo que es una necesidad a todas luces y supuestamente acabaría con la excusa principal

y eso es lo que acordamos en el mes de marzo y eso es lo que en estos momentos tiene sobre la mesa ura

también bueno desde luego nuestra primera opción sin ninguna duda sería que ura hiciera lo que acordó en dos mil doce ninguna duda y si ura

es lo que preferiríamos si ura realmente tiene esos problemas que hacen que tengamos que posponer la obra

mediante el dinero que adelante amvisa con una posterior devolución de ura de forma que acometemos

es bastante sencillo el planteamiento y la cuestión es que esperábamos con esta aprobación en marzo tanto en amvisa como en el ayuntamiento un pronunciamiento de ura y nos volvemos a encontrar con una cuestión que nos preocupa también en fechas recientes el director de ura afirma que no se puede

no ha realizado la parte que le corresponde y nos contestaba desde luego el ayuntamiento también ayer

y sí queremos desde luego que el gobierno nos aclare qué ocurre en estos momentos es una prioridad para realizarlo sí o no si es que sí demos pasos se puede acometer además la financiación desde el gobierno acometámosla acometámosla sin ninguna duda es un problema la financiación a corto plazo

porque adelantar el dinero es desde luego preferible a seguir gastando uno millón de euros cada año en tratar un agua que no se debería de tratar la cuestión yo creo que está muy clara la pelota está en el tejado de ura y ura tendrá que decir si realmente es el ayuntamiento el que no tiene

el ayuntamiento dice que es todo lo contrario que tiene todos los trabajos hechos la cuestión es que lo que no podemos estar porque unos piensan que los otros y los otros por los unos que todos seamos aquí los paganos de lo que está ocurriendo

la necesidad la disponibilidad y el acuerdo señores actúen eskerrik asko eskerrik asko larrion andrea sozialistak rojo andrea zurea da hitza

gracias presidenta y buenos días terminaba la señora garcía diciendo que hay que cumplir los acuerdos

y lo que no se puede manipular es ni lo que se está haciendo ni las inversiones económicas ni el compromiso que tiene la agencia vasca del agua

pidiendo el apoyo de los dos partidos que sustentamos al gobierno pues no vamos a apoyarlo

aunque creo que sí podríamos haber llegado a un acuerdo creo que lo hemos intentado todos no se ha podido y les voy a explicar por qué

en opinión de los socialistas en el territorio histórico de álava parece que pasa por convertir en el eje constante de sus críticas realizadas por otra parte sin ningún rigor técnico a la agencia vasca del agua da igual lo que se diga y como se diga

de buscar un culpable de situaciones tales como en este caso las inundaciones y aunque contado así con mucha ironía puede resultar hasta cómico a veces las cosas que dicen

porque hoy no es la primera vez que esto ocurre la importancia capital que su buena gestión tiene para cualquier ciudadano mucho más si contemplamos la realidad socioeconómica del territorio alavés hemos tratado de llegar a un acuerdo decíamos creo que además la señora lópez de ocariz lo ha intentado

a un buen acuerdo desde la voluntad real se está imprimiendo el departamento medio ambiente de ejecutar los compromisos que se adquieren señora garcía

todo ello en la búsqueda de soluciones a los principales problemas competentes para la agencia vasca del agua y nuestra máxima colaboración en aquellos problemas que aun no siendo de la agencia entendíamos importantes y necesarios para el territorio alavés para el guipuzcoano

al presupuesto que se encomienda en toda la comunidad autónoma presupuesto que por cierto algunos no sientan a negociar y parece que también la política del partido popular

y es una lástima que lo explote en el territorio histórico de álava y se lo dice una alavesa

y están creando un relato irreal que desde luego los alaveses no pueden creer el compromiso de ura con el territorio alavés está siendo una constante constatable en toda la legislatura

para el periodo dos mil diecisiete dos mil veintisiete para acometer inversiones en materia de abastecimiento y saneamiento recordemos una vez más de competencia municipal con un presupuesto de cincuenta millónes de euros por parte de ura cincuenta ni cinco

y en este punto les animo a que lo traten con el máximo rigor técnico que lo hagan por una vez

al tiempo que se respetan los hábitat de sus márgenes no convirtamos los ríos en tuberías porque no lo son los ríos deben estar vivos y así lo concebimos técnicamente desde ura

en dos mil doce recordemos que aquel acuerdo se firmó cuando el gobierno vasco

se nos dice que la inversión comprometida entonces se demora frente a la previsión de las obras que se hizo hace seis años

dos mil veintiuno dos mil veintisiete lo que se dice es que la agencia vasca del agua esta agencia vasca del agua va a completar dicho acuerdo y así lo ha expresado también el señor arriola no se habla de la importancia del hecho que la única obra contemplada en ese plan de gestión de riesgos

sea precisamente las obras de defensa contra inundaciones en el río zadorra comprometidas por ura

de que es un plan oficial publicado por el real decreto que como parece no gustarnos queremos obviarlo habrá que recordar que el plan de gestión de riesgos contra inundaciones del ebro es promovido por el gobierno central

del partido popular en españa y no voy a entrar a explicarle que la priorización de las actuaciones se realiza atendiendo a criterios técnicos de coste beneficio sí de coste beneficio no de interés partidista y electoral a un año de las municipales pero es un concepto lógico de entender al tratar el coste económico

frente al beneficio primeramente en el peligro en vidas humanas y en segundo lugar en pérdidas materiales

de las actuaciones lo que hay que destacar y dejar meridianamente claro es que el acuerdo firmado entre el ayuntamiento y la agencia del agua no ha estado cogiendo polvo en un cajón

en obras de defensa anti inundaciones en vitoria gasteiz inversiones que se incluye

el mantenimiento del entorno del puente gobeo la financiación y redacción de proyectos y obras ejecutadas por el ayuntamiento de vitoria en los ríos del sur

las obras de adecuación del soterramiento de entre las calles jacinto quincoces y alto de armentia

la redacción del proyecto de defensa contra inundaciones de los ríos batán y zapardiel

para la derivación de pluviales de saneamiento de errekatxiki al errekaleor

nada no hay inversiones no hay compromisos no ha habido gasto no hay nada

ura licitará en julio de dos mil dieciocho las obras del proyecto prevención de inundaciones del zadorra fase segundo actuaciones entre gamarra y abetxuko

y lo sometió a información pública previa a la aprobación definitiva que ha concluido este lunes o sea el lunes dieciséis de abril la tramitación ambiental está en marcha

por lo tanto el inicio efectivo de las obras sería previsiblemente a finales del dos mil dieciocho y finalizarán un año después o sea a finales

ejecución de las citadas obras se recuerda que las actuaciones ya realizadas en la pasarela y en el puente del antiguo abetxuko son trabajos

el siguiente compromiso de ura es la fase cuarto a la que hacía referencia la señora garcía

compete al ayuntamiento de vitoria esta fase cuarto no se contempla en el horizonte veintiuno porque no queremos mentir porque no podemos introducirlo si no podemos cumplirlo

es objeto de compromiso del ayuntamiento con otras instituciones entre ellas la diputación

en el mismo sentido y respecto a la ejecución de las obras de defensa contra inundaciones de los ríos batán y zapardiel tampoco se contempla su ejecución en el horizonte veintiuno de plan de gestión de riesgo de inundaciones pero ya cuenta ya está hecho

para su ejecución por la agencia vasca del agua ura y después de todo esto ustedes dicen que no estamos haciendo nada

hombre que no se está invirtiendo en el territorio histórico de álava es que es mentir

están los presupuestos de la agencia están los planes y además hay tres instituciones implicadas esto es lo que se ha realizado creo que no debiera obviarse no ha sido poco creo que no debiéramos hacer demagogia porque parece que nos rompemos las vestiduras

a pesar de todas ellas las crecidas de los ríos seguirán ocupando los campos en zonas inundables sobre todo en las cuencas no reguladas porque son eso

y porque lo entendamos o no el papel regulador de los embalses en tremendamente importante en la lucha contra las inundaciones pero no debiéramos olvidar que toda la cuenda del zadorra está regulada por embalses

sin entrar a tener en cuenta el plan de gestión del riesgo contra inundaciones

aprobada legalmente pues bien llegados a este punto sí lo décimos alto y claro estamos dispuestos a acometer esas obras a la mayor brevedad posible toda la velocidad que nos permita el presupuesto que disponemos y los criterios de priorización técnico ya expuestos así que en breve tendremos que negociar los presupuestos esperaremos sus enmiendas y sus votaciones

a explorar todas las posibilidades de financiación que nos permita señora larrion

no caigamos nuevamente en errores del pasado en esa mala costumbre de patada para adelante aquí lo aprobamos todo y luego ya veremos si lo cumplimos instemos a que tanto el gobierno vasco el ayuntamiento de vitoria

y a explorar las fuentes de financiación posible desde cualquiera de las instituciones

creo que este es un tema más que serio creo que el partido popular lo utiliza más de lo que debiera creo que debiera trabajarse sin demagogias sin culpables sin buscar réditos coyunturales porque creo que los beneficiados serán los alaveses y la provincia de álava y o debiéramos
creo que no falta ni un argumento para que entiendan el voto en contra de los partidos del gobierno a la enmienda que han acordado nada más muchas gracias eskerrik asko

berba egiten betetze mailaren inguruan baizik yo creo que todos los grupos tenemos claro que la solución a las inundaciones de vitoria pasan por las medidas incluidas en este convenio más allá de ese concepto un poco desfasado que tiene usted señora lópez de ocáriz de lo que

arrasar y pelar los cauces ese concepto está un poquitín superado la solución pasa

evitando así que pasen por el subsuelo de vitoria contaminándose con las aguas residuales

añadiendo cinco millónes de metros cúbicos al año sobre un total de treinta y tres millónes

un porcentaje considerable se ha puesto el foco en el debate anterior sobre el nivel del cumplimiento de este convenio se ha hecho una evaluación a nuestra opinión un tanto sesgada

dos años y medio existen en ella contempladas cuatro fases la primera ya estaba ejecutada efectivamente cuando se firmó el convenio antes del dos mil doce en la segunda fase han invertido un millón seiscientos mil incluyéndose una obra que no estaba

que tiene un régimen de protección media como el resto de los puentes

y se van a destinar en los próximos dos años un montante total de hasta cuatro millónes de euros para terminarla sobre la cuarta fase va a presentarse

se puede adelantar este presupuesto para empezar con las obras

y hay una tercera fase que se menciona en el convenio pero que no está recogido como compromiso para ura yo se lo voy a leer es muy breve

y qué pasó con esta financiación que debía venir de acuaebro

hubo conversaciones sobre el año dos mil catorce y lo que proponía

conceder un prestamo al gobierno vasco con lo cual

esa vía se ha cerrado no porque el gobierno no quiera o

no existe esa financiación y por tanto tenemos una

parada en el ayuntamiento desde el dos mil diez

haya otras instituciones que debieran entrar en ese convenio dado que existe la carretera nacional seiscientos veintidós que pasa sobre el zadorra es competencia de la diputación pero vamos que

el gobierno central eso está claro y en estos momentos está ausente por tanto

tenido conversaciones con el ministerio de fomento que nos explicara un poco qué calendarios manejan ustedes

en el dos mil doce en el citado convenio por último han firmado ustedes un cuarto punto podemos

que cita intensificando la colaboración con el ayuntamiento la definición final del proyecto de la cuarto fase de las actuaciones del zadorra y cuya redacción corresponde a este ente local según el citado acuerdo pues efectivamente y tal y como he podido escuchar anteriormente

larrion únicamente confirmar porque me consta de conversaciones recientes con el ayuntamiento de vitoria que este proyecto

me dice que mi concepto de limpieza de los ríos es muy antiguo

un árbol centenario cruzado es la típica de un cauce fluvial es la típica pues será en su pueblo no lo entiendo esto merece una limpieza y esto hace tapón

provoca inundaciones algo tan básico como eso pues eso señora rojo

me dice el partido socialista que no hay que buscar réditos electorales usted hoy me dice eso me sorprende igual tiene que ir al congreso y participar también en el debate

me habla de relato irreal relato irreal mire

antiinundaciones diputado general de álava ayuntamiento de vitoria señor urtaran señor ramiro gonzález

ura tiene que trabajar para dar cumplimiento a este acuerdo cuanto antes al acuerdo no me habla de planes hidrológicos que por cierto señor rojo los planes hidrológicos vienen derivador de la directiva marco del agua no los marca

no ustedes tenían la obligación de hacerlos y no lo hicieron y pendió una multa sobre el gobierno de españa por su no ejecución

decía el señor urtaran es el momento adecuado de pedir públicamente a ura que inicie cuanto antes la fase entre gamarra y abetxuko

tres años con el proyecto hecho y no hay presupuesto más relatos señora rojo usted ha firmado con el grupo popular iniciativas en esta cámara para la limpieza de los ríos no una varias

estamos como estábamos sin tocar los ríos y sin autorizar la limpieza para aquellos que lo quieren hacer y le he dicho lo que dicen los grupos

que la inundación puede ser evitada que la limpieza del cauce del zadorra no se ha ejecutado no se hace

de sus puntos le hablaba del abandono y de la suciedad de los ojos del puente que cruzan el zadorra desde abetxuko hasta trespuentes

mucho más rápido señora rojo eso no se ha hecho no se actúa en aquellos puntos críticos solo se ha ejecutado un veinticuatro por ciento del acuerdo se han hecho cositas pero eso no ha evitado que las grandes avenidas se desborden y que sigan inundando lo que inundaban

al pueblo de durana pregúnteles vaya a verlo un puente que había que modificar y que lleva

cientos y reuniones con los vecinos cientos para no hacer nada señora rojo y me habla de algo que me llama la atención el coste beneficio mire yo es que va a ser que este gobierno lo repite como un mantra balance coste beneficio para la inversión pública

en términos sociales económicos y ambientales están diciendo que priorizan las obras en función de la población afectada y ya nos dijo el señor arriola que quinientos habitantes

en vitoria no es ninguna prioridad entonces ustedes que opinan del desarrollo rural y del desarrollo sostenible no existen para ustedes

van a presentar usted de desarrollo sostenible que evalué que nadie se queda atrás

eso no les importa nada a ustedes no les importa el desarrollo rural es la población por esa regla de tres el señor darpon no tendría que tener ningún centro de salud en el territorio de álava solo en vitoria verdad y llodio no tampoco tendría que haber colegios

coste beneficio población que es lo que ustedes buscan pues nos quedaríamos vacíos mire tenemos que hacer un entorno rural

sin que tenga extorsiones permanentemente por la inacción de un gobierno el gobierno tiene que propiciar

a las zonas rurales para evitar la despoblación porque se están vaciando los pueblos y algo habrá que hacer

ustedes se centran solo en coste beneficio población yo pensaba que eso lo habíamos superado de verdad pensaba que estábamos en el siglo veintiuno pensábamos que estábamos apostando por un entorno rural amable

fuera y eso es lo que hacen ustedes para muchos pueblos del entorno de vitoria que ven inundados sus vías de comunicación permanentemente cada vez que hay una inundación señorías creo que tenemos que pensar más

y no solo en salvar la hucha del departamento de ura gastar en aquello que me interesa no en aquello que es prioritario para los ciudadanos
eso es lo que ustedes están haciendo eskerrik asko lópez de ocariz andrea elkarrekin podemos

es que no sé ni por dónde empezar

si no me hubiera coincidido con pleno igual hubiera ido se trata de interés político igual sino la situación no estuviera como está usted no hubiera ni tenido que empezar a intentar hacer la broma fíjese si fuera usted me hubiera callado usted hace

siempre utiliza a la zona rural quiere manipular

y la foto que nos ha traído con neumáticos botellas y todo eso

un acuerdo de limpieza de cauces que está firmado y funcionando es que el desconocimiento no exime de la responsabilidad no me haga así

que hay que ver que acuerdos se firman y que funciona y está firmada y funcionando por tanto

pero por favor no manipule usted no puede hablar del coste beneficio

como si ahora va a resultar que la situación de los ríos vascos son los responsables de que los pueblos estén más vacíos es que usted es demagogia

es que faltan a la verdad de todo no me ha respondido a nada de todo lo que le he dicho

en los temas del agua es que no es cierto nada de lo que dice y seguirán acercándose las municipales

a pueblo pero a ver si el gobierno de españa si no cae que va a caer pero si no cae

poquito y a usted le gusta mucho pedir aquí y en el otro lado le traen unas fotos que creo sinceramente que a usted le engañan creo que el tema de las obras

juntos creo que no debiéramos de mentir a los ciudadanos creo que tenemos que decirles que el presupuesto es el que es y ura señora lópez de ocariz

porque no se creó para eso y usted sabe que este tema se trató en amvisa pregunte cómo concluyó el debate en el ayuntamiento porque ni la foto es actual ni lo que usted nos ha contado es verdad no es verdad

es que en el ayuntamiento y la diputación que las cabezas son del pnv dicen que con urgencia que cuanto antes se hagan las obras claro claro yo también se lo he dicho en mi primera intervención que estamos de acuerdo

que esta la característica coste beneficio que hay un presupuesto que hay una planificación que hay alguien más que opina aparte de ura

un poco de criterio técnico un poco de seriedad y no manipular porque detrás de esa gente que usted dice que se preocupa tanto que es la gente de los pueblos

por supuesto hay unas inversiones que el señor arriola defendió desde la comparecencia primera cuando empezó la legislatura hasta la última comparecencia en los últimos presupuestos por cierto que ustedes votaron a favor porque parece que ustedes han llegado aquí en una nave espacial y se han encontrado con un presupuesto

con los apoyos no sé de quién porque el primer acuerdo para estas inversiones fueron del dos mil doce con el lehendakari lópez a la cabeza

y usted miente descaradamente con el tema de las obras hidráulicas no se pueden crear falsas expectativas no se le puede decir a ciudadano que sí

podría haber firmado podríamos haber votado por puntos incluso pero me parece que hay veces que hay que decir la verdad porque aquí yo no vengo a ganar votaciones

y usted vuelve a utilizar el tema de las obras hidráulicas y nunca miran nunca a la responsabilidad

cuando la demagogia es el único elemento que se utiliza para hacer política uno deja de ser creíble y usted hace demagogia

sabe usted igual que yo que yo aceptaba tres de los cuatro puntos íntegros de lo que usted proponía sabe que lo que yo pedía al partido

era usted entiendo que bildu siendo solo euskadi no quisiera pero usted

termino señora presidenta diciendo el gobierno vasco con el departamento del señor arriola

existe una planificación existe un presupuesto y existe colaboración entre las tres instituciones implicadas pero creo creo que estando la política en el nivel que está

lo que usted sabe que no se puede hacer eskerrik asko rojo andrea

buenos días señora presidenta buenos días a todas y a todos badago tximeleta mota bat jaio eta berehala hil egiten dena

igualdad de oportunidades no hay igualdad de oportunidades para acceder a puestos de responsabilidad en la redacción de e i te be porque todos absolutamente todos son cargos de confianza que generan ese círculo perverso de

te quita sin mayores explicaciones ni tampoco reparaciones y para muestra de que ese es el quid de la cuestión me remito a lo que en el dos mil dieciséis el partido socialista instaba aquí en esta cámara decía entonces que en tanto se produjera la reforma integral del servicio público con criterios de profesionalidad e independencia en la designación

en la designación de los responsables de los programas informativos bajo criterios de transparencia e igualdad de oportunidades transparencia e igualdad de oportunidades eso es lo que pedía lo que transaccionó entonces con el pnv en cambio fue que se impulsara

fueran escogidos con criterios profesionales punto

romper con inercias de años con la autocensura pero el hecho de impulsar una carrera profesional basada en la igualdad de oportunidades es ya

a debate la importancia de contar con unos informativos en e i te be que hagan de la objetividad la imparcialidad y el respeto del pluralismo político su seña de identidad un tema que nos ocupa y nos preocupa y mucho

en la comparecencia de la directora general en la comisión de control ya abordamos esta cuestión con detenimiento así que hoy no me voy a extender mucho

de aquella comparecencia es que la mayoría de los partidos con la excepción como no del pnv tenemos dudas cada una con sus matices

con la ley de creación de e i te be sobre los principios de objetividad imparcialidad y el respeto al pluralismo político también quedó en evidencia al entender de nuestro grupo

también tienen relación directa con los tiempos que se dedican a los mismos al gobierno y a los partidos políticos los datos como dijimos son bastante elocuentes vistos en su totalidad y no de forma aislada el tratamiento que recibe elkarrekin podemos en e i te be no es el que le corresponde y esto son objetivos la dirección de e i te be sigue nombrando a dedo cargos de confianza como ya todas sabemos es una práctica que nosotras no compartimos en modo alguno ya que nuestro modelo para e i te be apuesta decididamente

todos los cargos tanto de las personas directivas como de las jefaturas se escojan en base a criterios de profesionalidad libre concurrencia transparencia e igualdad de oportunidades

en europa y en otros lugares del mundo solo así

a recibir información plural objetiva e imparcial sea garantizado de manera incondicional dejando en manos de las personas profesionales la elaboración de la información algo que es del todo imposible con el sistema de gestores actualmente vigente sin embargo en la última comparecencia de la señora

no encontramos ni un atisbo de autocrítica ni la más mínima señal de que tenga intención de cambiar su sistema de elección ya sabemos que su cómoda interinidad está al servicio de que no haya ningún cambio en e i te be

es decir cero crítica con esta iniciativa le vamos a pedir de nuevo que cambie de rumbo y que haga de una vez por todas

carrera profesional y garantizar que los informativos de e i te be dejen de estar al servicio de la información gubernamental

que volverá a hacer caso omiso hay una larga experiencia sobre estas cosas ella sabe muy bien cuál es su tarea

con la dignidad y los derechos de las personas profesionales de e i te be y de los de la ciudadanía nosotras en cualquier caso vamos a seguir insistiendo y defendiendo otro modelo tanto en lo que se refiere a los informativos como a e i te be en su conjunto

no son las personas adecuadas no son las personas adecuadas para afrontarlo fundamentalmente porque no quieren agradecemos a bildu que haya aceptado nuestra enmienda de edición con la que hemos querido destacar dos cuestiones

de alta importancia y otra que se asuma un compromiso de implementar las medidas acordadas en un plazo razonable de tiempo de tres meses besterik ez

presidenta buenos días de nuevo a todos la verdad es que yo

bastante similar a esta ya la tratamos en el pleno de marzo y también porque tuvimos una comparecencia

de los informativos de e i te be decía la señora arana que la directora de e i te be cero autocrítica bueno es que esperar de la dirección de e i te be alguna

y siento lo que porque algunos ya me lo oyeron el otro día en la comparecencia

en el pleno anterior pero las comparecencias o las intervenciones de la señora directora de la señora iturbe pues

vendo mi libro y poca contestación a lo planteado por los grupos no es que no conteste

hace una conferencia en dos tiempos siempre porque

y ya lo de responder a lo que plantean los grupos pues bueno eso ya

verdad y vender su libro es señalarnos

aparecen recogidos como principios la pluralidad y objetividad en la información que es cierto efectivamente

así como la distinción y separación entre información y opinión la cuestión es no que aparezca

en la ley de creación del ente la cuestión es si ese artículo concretamente en e i te be se cumple porque se lo dije el otro día la señora directora con que aparezcan en la ley no es suficiente

la objetividad se la dan como pretende en muchos casos el que sean los teleberris que más audiencia tienen ser los más vistos

no implica que sean los más objetivos y tampoco se mide como se ha pretendido decir cuando se ha dado cuenta del cumplimiento programa por ejemplo el otro día

que son informativos de calidad y se sigue un criterio absolutamente cuantitativo porque lo que se establece es el número de horas

la calidad la objetividad la imparcialidad no se mire por el número de horas sino por el contenido por la calidad de lo que aparece contenido en ese número de horas y no lo hemos dicho solo

publicitarios gratuitos del gobierno hay consejeros que pudieran pasar por presentadores verdad de las veces que sale uno ya acaba confundiéndolo y la mezcla entre información y opinión

con relación a los profesionales en el preámbulo de estatuto de redacción de la radiotelevisión pública vasca

las personas profesionales de la información de este ente público deben considerarse y actuar

de desarrollar estos derechos de tal manera que su principal deber profesional sea informar independencia rigor y objetividad con respeto a los principios editoriales y contenidos

vasca euskal irrati telebista proporcionará a la ciudadanía una información basada en la veracidad de los hechos la consulta de todas las fuentes el rechazo de toda manipulación y el respeto a los principios de éticas profesional de periodismo plasmadas por la unesco el consejo de europa y la federación internacional de periodistas por lo tanto es necesario

y el contenido de lo que hoy vamos a debatir y votar aquí es importante para garantizar esa independencia para que lograr ese objetivo es necesario que los profesionales de e i te be vean reconocidas su carrera profesional

iniciativa independencia informativa y carrera profesional son dos conceptos necesariamente relacionados y tal y como ha dicho la señora agirre lo que no puede hacer es que la carrera profesional de un periodista empiece y acabe el mismo día o sea no tiene

que quien se encargue de fijar la línea informativa los que deciden los contenidos sean elegidos por criterios profesionales por mérito por capacidad y con igualdad de oportunidades porque si al final esos puestos son siempre todos cargos de confianza se corre el riesgo que su elección se haga por criterios

y si no le gusta lo que haces pues igual que te ha puesto te puede quitar y

en etb hay mucho lo hemos dicho en otras ocasiones y lo queremos reiterar hoy aquí e i te be está instrumentalizada es un medio al servicio de un posicionamiento político concreto y de unos fines políticos determinados de uno más general

quien gobierna impone sus criterios políticos y eso no lo digo yo eso se dijo aquí por el portavoz del partido nacionalista vasco cuando intervino en el pleno de ocho de marzo tratando precisamente de la independencia de los informativos pues como el señaló

sus criterios de lo que se trata es de que no sea así y que realmente e i te be sea puntera por dar una información veraz independiente en la que sus profesionales tengan derecho

presidenta me ha ayudado un poco más la señora arana a centrar el debate porque

es verdad que fue tratada en marzo es verdad que la hemos vuelto a tratar

en la comisión de control pero hemos acabado hablando

otros acuerdos que se habían tomado en otra legislatura casi siempre en esta tribuna para arrojárselo a la cabeza a otro

no para construir ninguno nadie ha hablado sin embargo de la carrera profesional bueno sí creo que lo ha mencionado

que está dentro de los acuerdos consensuados por todos los grupos de la cámara a tratar de manera participada además dentro de la ponencia de e i te be eso me parece que lo ha señalado al final y así lo digo pero de lo demás

antes la señora arana yo creo que todos

se dijo que es necesario hacer una reflexión de la radio televisión pública vasca en su función de servicio público que tiene obviamente esas funciones de objetividad imparcialidad

y transparencia en la formación y la información que dan sobre todos también ahora que hablamos

y eso es una de las palancas de la ponencia de reforma de e i te be y lo hemos compartido todos y todas porque además hacemos referencia siempre siempre siempre a dentro del servicio público que el mismo sea desempeñado

se da la garantía de un mejor cumplimiento de una garantía total porque yo creo

la transparencia y la financiación también serían

en fomentar esa carrera profesional con todas esas características que han señalado las portavoces anteriores

y en ese algunos compartimos qué es lo que resta eficacia al desarrollo de la carrera profesional y no estamos de acuerdo con el mismo y lo vamos a reiterar y otros grupos que no lo consideran de esta manera

dentro de la ponencia de reforma porque si fuese tan fácil lo hubiéramos hecho antes sí de verdad solo sería apoyar la carrera profesional sin detallar

en lo que no estamos de acuerdo y cómo vamos a suprimirlo o a modificarlo pues supongo que ya no sería una de las cuestiones que tenemos que abordar en

integral yo no creo que solamente es eso insisto

hablo de otro modelo hablo de gobernanza de transparencia y financiación y del servicio público y dentro esta priorizar y proyectar la carrera profesional de los y las profesionales de e i te be pero hay otras cuestiones que no entonces vuelvo a decir una iniciativa presentada hace un año la traemos aquí

de ley para que otra vez vuelva a salir e i te be y en este caso los y las profesionales dentro

cuando hay un acuerdo en tratarlo en la ponencia en llevar a todos los sindicatos

en el propio ente y en euskadi a participar con nosotros de ese análisis

para echarnos los trastos a la cabeza y en medio los y las profesionales del ente pues sea o no mariposa lo que no vamos a hacer es convertirlo en un ogro desde luego no va a ser nuestra intención yo lo dije

un acalorado debate con la señora arana no pasa nada si no queremos hacer en la ponencia si vamos a traer cada vez una iniciativa

estamos preparados preparadas seguro que no están de acuerdo con nuestra propuesta o sí lo están en cada uno de esos ámbitos que tenemos que trabajar pero

para hacerlo dos veces para salir en los medios de comunicación tratando de manera negativa al ente porque al final contribuimos a eso y en este caso además

yo desde luego no estoy dispuesta la única razón por la que nosotros no compartimos esta iniciativa

de manera consensuada y participada porque finalmente todos los grupos llegamos a un acuerdo para que esa reforma fuera participada como viene también

a ese acuerdo de que estén los sindicatos representantes de esos profesionales de esas profesionales en esa ponencia integral

finalmente por la iniciativa política la agenda política

y todas yo lo que no haré será decir lo contrario pero me gustaría que se aclarara cuál va a ser porque si no

lo dividimos hacemos proposiciones

o no de ley yo apostaría más por las de la señora arana de ley ya si se trata de romper la ponencia y abordar por trozos las cuestiones que queremos

nosotros no creemos que traer a etb únicamente a debatir y a poner

las cuestiones políticas y las diferencias que existen cuando tenemos un marco que además lo tenemos consensuado

expresamente pactado la carrera profesional la comparecencia de los sindicatos la participación no nos parece

tenemos a llevarla a la cámara a partir de ahí obviamente no voy a empezar a sacar acuerdos en los que estaba el proponente que luego se le ha olvidado y no ha respetado de e i te be porque no se trata de lo que hizo en ese momento

que podríamos sacar o no sacar o lo que hizo el partido nacionalista vasco lo que hicimos nosotras o lo que hizo el partido popular el tema es que estamos en una ponencia y lo teníamos que queremos reformar todo eso y más en concreto en este tema hay pocas discrepancias bueno hay alguna pero no es precisamente entre usted y yo entonces de verdad no entiendo en primer lugar

del debate de la ponencia una vez más este tema cuando existe un acuerdo amplio y en segundo lugar

alguien coja los acuerdos para echárselo a la cara a algunos de los grupos al mío u otro como debo de ser coherente

no le voy a echar a nadie en cara nada y solo espero que sigan trabajando en la ponencia en breve comparecerán además creo los sindicatos ya se está contactando con ellos para ese desarrollo de la carrera

que es el sistema entre otras cosas el sistema de gestores cómo afecta eso también al desarrollo de la carrera profesional quién lo estableció quién lo apoyo habrá muchas cuestiones pero no solo será esa yo estoy convencida que no solo será esa y por eso quiero hacerlo allí dialogando participando y contrastando con ustedes

otro modelo de e i te be porque a ver si de lo que se trata es de que finalmente no lleguemos a tiempo con iniciativas parciales para poner

antes de que acabe esta legislatura cuáles son los modelos de e i te be que defendemos no las iniciativas particulares muchas de ellas compartidas sino los modelos de e i te be

al margen de iniciativas concretas no son tan diferentes con los que ahora existen

invito a lo mismo si en otro caso no quieren que esto se trabaje en la ponencia

todos los días no puede ser que estemos tratando dos veces la misma cuestión yo creo que se puede hacer una iniciativa política

que traer al debate político y a romper los consensos en este parlamento una cuestión que estaba francamente muy bien avanzada gracias eskerrik asko

esta era los debates de otros días efectivamente el día ocho de marzo

del día de la comparecencia de la directora general en la comisión de control de la semana pasada

habla de la carrera profesional de la promoción de los profesionales de los profesionales de dentro de la casa dentro de la propia

la señora romero yo creo que estamos todos de acuerdo en que la carrera profesional es importante en que tenemos que trabajar en esa carrera profesional y lo hemos puesto en algún sitio lo hemos puesto

de discusiones a veces acaloradas pero hemos llegado al acuerdo

de trabajar todo eso en el marco de una ponencia donde ya tenemos una metodología donde estamos trabajando y donde tenemos que ir adelante con la definición entre otras cosas de esos parámetros de carrera profesional pero también

que la carrera profesional aquí se habla mucho de la promoción de las posibilidades de promoción la señora agirre además desde un conocimiento muy directo y muy interno de la cuestión pues

yendo al portal de transparencia de la propia casa yo me encuentro con que hay

más del ochenta por ciento de las personas que están en cargos de responsabilidad o que tienen diferentes

pues provienen de la casa tanto en etb como en irrati como en eitbnet pues me encuentro con que del ochenta y cinco por ciento para arriba

con que son personas que vienen de la propia casa y que han tenido un desarrollo profesional es más y también sigo con el portal de transparencia de etb

alguna de las portavoces de este ámbito

es que dan una foto bastante distinta de la que nos quieren mostrar algunos

pues viene de la casa la propia maite iturbe está desde el año ochenta y cuatro lanean etbn

yo no he dicho que no sea gente de la plantilla la que está en cargos de responsabilidad lo que cuestiono es cómo se elige a esa gente qué

que sea de calidad la gente lo eligió la vio pero

mira si soy responsable que me tomo todo muy en serio y también la ponencia de e i te be

mire si soy seria pero mire ya que le gusta tanto hablar de la ponencia

el debate bajo nuestro punto de vista es pertinente ahora y siempre

porque las comparecencias de la ponencia son a puerta cerrada y eso

no lo toleramos porque creemos que la participación tanto de la ciudadanía como de las personas expertas sindicatos etcétera deben ser públicas y ustedes o las y los que votaron en contra

por qué no quieren todavía están a tiempo de rectificar si es lo que desean habla de encuestas

creemos repito tiene derecho a participar del debate

de la radio televisión pública vasca de todas y de todos pero también de todas que están olvidadas en esta radio televisión pública vasca que tenemos actualmente creo que tienen derecho a participar en ese debate y tienen derecho también a decidir y decir

quiere y no se lo estamos permitiendo porque insisto

son a puerta cerrada a la ciudadanía se le está impidiendo poder participar de este debate entonces es pertinente que hagamos los debates en el pleno sí porque por los menos la ciudadanía así podrá escucharnos y así podrá saber

luego cada una sabrá lo que hace besterik ez eskerrik asko

gracias de nuevo yo también voy a ser muy breve

nosotros fuimos uno de los promotores de la ponencia y creo que lo he dicho en alguna otra ocasión es verdad que

que la ponencia no puede ser el parapeto para que determinadas iniciativas o determinadas cuestiones sobre e i te be no se traigan a esta cámara

sobre un determinado asunto y ya no se vuelve a debatir pues podemos vaciar el pleno además y en eso coincido con la señora arana y yo estando de acuerdo

sean debates que queden allí dentro me puede parecer bien pero precisamente por eso es verdad que hay determinados asuntos que creemos que por la relevancia o porque

adecuados que tengan luz y taquígrafos se traigan a esta cámara

poner en cuestión al ente ni a los profesionales del ente entre otras cosas porque eso al final también es perverso es decir cuando alguien habla

uno poniendo en cuestión a e i te be no no a lo que está poniendo en cuestión es a la dirección de e i te be en este momento a cómo está dirigida e i te be en ese momento que nada tiene que ver con cuestionar y precisamente creo que todos en esa ponencia lo que pretendemos es un nuevo modelo de e i te be que se acerque más a los principios de lo que tiene que ser

impuestos se vean reflejados y

en mi primera intervención es que la calidad de la información en los informativos en e i te be

se refleja cuantitativamente o sea se dice número de horas y como hay muchos números de horas de informativos entonces ya los informativos tienen una calidad tremenda eso y luego las encuestas que se realizan

la señora agirre muy bien porque son los de aquí yo lo he dicho también en muchas ocasiones

ver lo que sucede en euskadi lo cual no quiere decir que le guste ver lo que hace el gobierno a todas horas mañana tarde y noche porque ya le he dicho algunos consejeros podían formar parte de la plantilla del ente mire igual para sus cargos directivos también los podrían nombrar porque claro aparecen continuamente y es que se lo he dicho a la señora agirre es diferente que se elija

y muchos y muy buenos y otra cosa es que se haya accedido

entre los profesionales del ente pero a dedo y el otro día en el consejo de administración tuvimos la ocasión de nombrar un cargo más en el que nosotros

de la persona era una elección de la dirección del ente

pero elegido a dedo yo creo que la cuestión es

yo no digo que tengan que desaparecer todos los cargos de confianza pero la cuestión es que los profesionales tengan igualdad de oportunidades exista una carrera profesional

en determinadas ocasiones porque quien está ahí realmente está por méritos propios y no porque ideológicamente

gracias señora presidenta sí al menos aquí tenemos ponencia y estamos debatiendo sobre cómo mejorar el servicio público

de la radio televisión pública vasca cosa que no sucede precisamente

pública en españa fijaros qué casualidad eso es lo que no ocurre

un poco de suerte y un poco de apoyo y podemos cambiar esa cuestión

momento es hasta un determinado momento porque yo puedo entender la crítica sobre si solo en la ponencia fuera de la ponencia puedo debatir con aquellos

que me hable de pluralidad informativa calidad en los servicios de información y participación para modificar

lo van a intentar hacer mejor espero que sí porque desde luego su contribución en la ponencia sí es cierta desde la presentación desde la iniciativa cosa

desde luego el partido socialista ha hecho una propuesta siempre lo ha dicho fuera y dentro del parlamento el primero que hizo una propuesta de reforma de e i te be

de eh bildu podemos tiene la suya y estamos trabajando otra conjunta

no hemos puesto ni un obstáculo ni uno en la ponencia hemos votado

también votamos a favor de eso y del acuerdo de participación con la upv de todo ni un obstáculo o sea que de esconderme yo nada de participar siempre

también porque son las mismas que usted no me ha dado porque si hubiera hablado de lo que venía a hablar le hubiera dicho que comparto desde la primera hasta la última línea de la justificación de su iniciativa

que es una cuestión que efectivamente mejora la calidad del servicio público de la radio televisión pública vasca pero también debe ir acompañada con otras cosas que estamos tratando y que me diga a mí que no le doy argumentos pero si les doy siempre el mismo argumento

y nunca he ocultado ni cuál es la propuesta que tenemos porque la tenemos el problema es cuando todavía no sabemos cuál es la propuesta que tenemos

y lo décimos en genérico para que lo trabaje e i te be o no y para que no lo trabajemos todas nosotras dentro de la ponencia con la participación de los agentes sindicales y del resto de la ciudadanía que hemos acordado a través del proceso participativo con la upv por lo tanto ese es el problema por qué lo tiene que hacer solo la dirección de e i te be con un grupo cuando nosotros queremos preocuparnos por cómo es el servicio público

por qué no podemos ocuparnos de eso y por qué no podemos ocuparnos

estándares que queremos y por qué no podemos ocuparnos nosotros también en la ponencia de que los y las profesionales de e i te be merezcan

eso es lo que he dicho y esas son razones fundamentales para saber que yo tengo propuesta y que yo la voy a defender muy clarita cuando acaben los trabajos de la ponencia otra cuestión es no tenerla o tener una parte sí y otra parte no y no poder decirlo y hacer una iniciativa en concreto muchas gracias

ardura daukaten profesional gehienak etxekoak dira son de la casa

bien primer avance ya sabemos que la mayor parte

que están en tareas directivas o de responsabilidad dentro del grupo e i te be son personal de la casa el problema es según también la señora jasone

cómo se eligen o con qué principios bueno los principios por los que se elijen están marcados están marcados en los diferentes documentos

las funciones de e i te be pero perdón me estaba despistando un poco con tanto tráfico

tampoco hay que dramatizar y tampoco hay que demonizar

y también existe en los ayuntamientos en los gobiernos en todos los sitios en todos los ámbitos de la administración en determinados sitios y para determinadas cosas

la ponencia como habíamos hablado por qué se trae hoy aquí este debate para qué traemos este debate aquí

para manifestar desacuerdos para que quede claro que todos estamos de acuerdo y que vamos a seguir trabajando en la ponencia tenemos una ponencia

necesitamos sacar cosas de allí para qué para que lo oiga alguien quién es el destinatario de este debate de hoy señores de eh bildu quién es algún sindicato

que es que la señora arana no sabe muy bien lo que es la democracia no

la ponencia se creó por mayoría con una amplísima mayoría si no sumo mal cuarenta y seis sobre los setenta y cinco de la cámara

que no es que sea secreta es discreta es discreta para poder avanzar para poder debatir de otra manera para poder trabajar determinados temas y usted sabe como le ha dicho la señora

que estábamos de acuerdo todas además todas en hacer

entonces no me diga que es que la ponencia no sé qué secretos tiene y entonces tiene que traer aquí las cosas no

lo que quieren es enredar y traer sacar aquí determinadas cuestiones para poder tener fuera

de determinadas maneras metodología

tejiendo confianzas trabajando en positivo que eso es la ponencia con sus gorabeheras pero eso es la ponencia y en eso estamos pues no rompes la metodología trayendo las cosas a otros ámbitos

así lo hacemos en otros ámbitos cuando se quiere trabajar cuando se quiere avanzar cuando se quiere decidir y cuando se quiere acordar se respetan las metodologías aprobadas por una amplísima mayoría y diría en este caso la metodología por consenso porque en metodología al final nos pusimos de acuerdo todas eskerrik asko

debido a nuestra persistencia por promover un salto cuantitativo y cualitativo en políticas de igualdad y violencias machistas en todos absolutamente todos los ámbitos de la vida y por consiguiente se deben impulsar medidas desde todos absolutamente

públicas medidas para prevenir atender proteger reparar y tener garantías de no repetición de todas las violencias machistas volvemos a recordar que las violencias machistas son mucho más que la violencia ejercida por pareja o expareja que son mucho más de la agresión sexual que se da en las calles que la discriminación

y los prejuicios son también caldo de cultivo para múltiples formas de violencia o vulneración de derechos a veces por acción

otras veces por omisión de forma indirecta porque tenemos instaladas prácticas que no nos hemos detenido a analizar desde una perspectiva de género

son mucho más difíciles de ver o identificar aunque no pongan en riesgo la vida de las mujeres aunque sean menos alarmantes aunque pasen desapercibidas también son violencias que se deben prevenir y las instituciones tenemos la obligación de poner coto absolutamente a todas

desde el chiste hasta la más grave e irreversible violencia como es el feminicidio las mujeres van a continuar el camino y ya no hay marcha atrás van a continuar destapando analizando y sacando a la luz denunciando y proponiendo aunque algunos no lo quieran ver desde las calles desde la academia desde las instituciones desde los lugares de trabajo desde las casas las mujeres plurales y diversas están articulando a nivel mundial

temas para este tiempo esta realidad y el futuro que queremos en este contexto las mujeres y el movimiento feminista vasco están siendo una referencia a nivel mundial

es que la próxima sede del encuentro internacional de la marcha mundial de las mujeres es en bilbao aunque este encuentro internacional e histórico hoy por hoy no esté

rugby o baloncesto en octubre les guste a muchas y a muchos o no las calles de euskadi

mujeres que son referencia política y social en sus países y en todo el mundo y todo esto es importante mencionarlo

cómo surge y por qué presentamos esta iniciativa los estudios y las políticas de seguridad estuvieron durante años ciegos al género y a su vez los estudios de género estuvieron ajenos a las políticas de seguridad las mujeres feministas

porque consideran que es algo muy importante se está desarrollando conocimiento los niveles y como no podía ser de otra manera de una gran profundidad conocimiento que revisa desde los marcos y paradigmas del concepto de seguridad a nivel de naciones unidas hasta las prácticas cotidianas de comisarías en diferentes lugares del mundo la seguridad y las instituciones encargadas de la misma como la policía son una pieza aunque no la única para la prevención y erradicación de las violencias machistas y también es un actor que como decía antes por acción u omisión porque tal vez y esto es así no se ha dedicado el tiempo necesario para reflexionar y analizar desde una visión de género sus actuaciones pueden reproducir estereotipos

en el estudio que mencionábamos en la justificación de esta iniciativa se dice por ejemplo que las personas entrevistadas admiten no haber reflexionado nunca sobre el impacto que provoca una experiencia de detención mucho menos desde una perspectiva de género la reflexión está iniciada y ya no hay marcha atrás

desde distintos lugares del mundo para analizar y revisar

se impulsa en euskadi el estudio que acabo de mencionar se titula experiencia de la detención policial en las mujeres de la comunidad autónoma del país vasco la directora

zuloaga estíbaliz de miguel y miren ortubay es un trabajo que

lo que hace es analizar desde una perspectiva de género la experiencia de las mujeres que han sido detenidas en el periodo entre dos mil once y dos mil dieciséis

en una sociedad que genera desigualdad en un sistema patriarcal que tiene ampliamente extendidas prácticas basadas en estereotipos sobre lo que es ser mujer y lo que es ser hombre sobre cómo debemos comportarnos unas y otras en esta realidad es decir

u hombre en el proceso de detención policial las autoras comparecieron en este parlamento a petición de elkarrekin podemos y con mirada crítica y también

quiero señalarlo porque me parece importante con mucho respeto presentaron con más detalle el estudio todas las que estuvimos en esa comparecencia pudimos comprender

y nosotras entendemos que el estudio y el problema que se ha identificado no puede quedarse en un cajón tenemos la responsabilidad de continuar la marcha cuanto antes

entendemos que hay que abordar la igualdad y las violencias machistas desde todos los ángulos con absoluta profundidad y desde todos los departamentos del gobierno vasco

no olvidemos que los principales organismos internacionales han expresado en diferentes ámbitos y a través de instrumentos diversos la necesidad de estudiar y analizar la situación penal de las personas desde una perspectiva de género así como diseñar

en el año dos mil se firmó la declaración de viena sobre la delincuencia y la justicia en la que los estados miembros de las naciones unidas se comprometieron a formular recomendaciones de políticas públicas orientadas a la acción y basadas en las necesidades especiales de las mujeres en su calidad de reclusa o delincuente una década más tarde se acordaron las reglas de las naciones unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes

en definitiva creemos que sobran los motivos y está ampliamente consensuado que es imprescindible incorporar perspectiva de género a las políticas de seguridad

enmiendas las estudiamos las analizamos hemos intentado como siempre hacemos recoger todas las inquietudes

y obviamente siempre teniendo en cuenta que siempre se puede dejar algo en el camino es decir predispuestas

pero queremos como digo llegar a acuerdos queremos que las iniciativas sobre igualdad y violencias machistas salgan adelante y a veces pues nos encontramos con muros la enmienda final que invito a releer y reconsiderar a los grupos que

hoy votar en contra recoge estas propuestas que son todas de sentido común y sobre todo tan necesarias como está demostrado en estudios y recomendaciones internacionales no es algo que nos inventamos nosotras y también en ese estudio que tenemos

primero proponemos que se elabore un plan para incorporar la perspectiva de género de forma transversal en las políticas internas y externas de la institución policial

y que por supuesto se haga en el marco de plan de igualdad del departamento de seguridad alguien puede decir que no a esto

a alguien de esta cámara que esto no es necesario dudas en el segundo punto proponemos que se analicen concretamente las recomendaciones emanadas del informe experiencia de la detención policial de las mujeres de la comunidad autónoma del país vasco

tercero y también dentro del plan que proponemos en el punto uno proponemos que abran líneas de trabajo para prevenir desde una perspectiva de género posibles actuaciones injustas

reproche penal o social basados en estereotipos y prejuicios de género que como ya sabemos lo he dicho pueden ser por acción

porque nunca nos hemos parado a reflexionar y analizar pues creemos que ya es hora todavía están a tiempo de pensar si esto es necesario o no lo es también para que se desarrolle en el plan proponemos un programa de atención y acompañamiento

este programa tendría en cuenta todas las dimensiones de una detención como puede ser el trato los registros personales las instalaciones

medidas relativas a la salud a las niñas a los niños en definitiva

es decir proponemos que se avance y se mejore el cumplimiento de las recomendaciones internacionales

parece que no en el quinto punto proponemos que se elabore un protocolo para la prevención detección precoz protección de víctimas y denunciantes

o abusos sexuales en todos los ámbitos de detención estos protocolos por si no se sabe están establecidos por la ley

emakunde publicó una guía actualizada hace tan solo dos años por qué no liderar y ser modelo por qué el gobierno no quiere ser modelo de todo esto desarrollando los protocolos en toda la armonización pública

sean modelos de lo que ustedes proponen pero parece que esto tampoco quieren

las intervenciones policiales y detenciones que se producen en los casos

en el marco de situaciones de violencia de género o violencia machista ejercida por parejas o exparejas tampoco les parece importante investigar las denuncias cruzadas y lo que está sucediendo la verdad que no lo entendemos

y solo planteábamos que se cumpla tampoco están de acuerdo y por último para todos los puntos que se cuente con las instituciones competentes del ámbito local

y contar con la participación de agentes sociales y profesionales expertas en la materia tampoco como pueden ver una enmienda

todas las aportaciones de todas las fuerzas políticas y todas con sentido común pues tal vez

porque los grupos del pnv y sus socias del gobierno

y el pp parece que van a votar en contra me gustaría escuchar lo que tengan que decir al respecto estamos muy interesadas en sus explicaciones

posible voto en contra pese a que hemos incorporado las propuestas de todos digo todos los grupos que hicieron el trabajo y presentaron enmienda besterik ez eskerrik asko

y la selección penal no tiene únicamente un marcado carácter de clase social sino también de género y otros ejes de desigualdad social tiene que ver con lo que cada sociedad

de esta sociedad entienden por punible

por castigable y por qué perfiles por qué identidades por qué vivencias cuáles son las que creemos que son punibles

a todos y a todas efectivamente creo que en este tema estamos de acuerdo señora arana

de tener en cuenta el informe que se presentó el catorce de marzo en una comparecencia del parlamento creo que estamos de acuerdo en la preocupación que todas y todos tenemos en esta cámara por actuar

de la parte más propositiva me parece a mí porque

de la transacción que va a votar tanto podemos como eh bildu habla de hacer un plan del plan hablan del plan de igualdad pero se quiere crear otro plan cuando el plan ya existe entonces a mi lo que me parece es que compartiendo la preocupación

teniendo en cuenta que estamos en la mitad de una legislatura en la que todas las semanas tratamos un tema relacionado con la necesidad de ahondar en los derechos de igualdad sabiendo que

en el calendario legislativo existe una propuesta de ley para abordar el tema de las violencias machistas de las que también hemos venido a hablar y que siempre salen a colación en todos los temas estamos a las puertas de seguir avanzando y yo creo que la igualdad

no tangencial está en todos los departamentos del gobierno y yo creo que también está en el departamento que dirige la consejera de seguridad en el informe que se presenta el catorce de marzo se habla de un ámbito intermedio del que hablaba la señora

es verdad que se ha ahondado mucho en lo que tiene que ver con las cárceles

de lo que yo he podido leer de ese informe porque yo no formé parte de esa comparecencia

y propositiva se reconoce que se están haciendo muchas cosas incluso en la parte final del propio informe cuando las propias

las que lo han redactado plantean dos propuestas concretas de forma textual dicen son aportaciones valiosas en la medida en que surgen de la vivencias de las propias mujeres que han sufrido detención pero resulta evidente y ponen en negrita su puesta en práctica resultaría complicada e incluso cuestionable determinados puntos por eso en la enmienda transaccional que firma el partido nacionalista vasco y el partido socialista se habla de analizar en el marco del plan de igualdad del departamento de seguridad las propuestas emanadas del informe experiencia en la detención policial en las mujeres de la

las mismas en su ámbito de actuación no es que no estemos de acuerdo en la necesidad de actuar lo que queremos es actuar bien actuar en forma ver cómo se pueden llevar a cabo muchas de las cosas que planteaban quienes vinieron a comparecer

adaptarlo a lo que ya tenemos el segundo punto que nosotros proponíamos era

así como las correspondientes evaluaciones del mismo si no ponemos en valor los planes que ya tiene el gobierno si no analizamos cada una de las actuaciones que ya están puestas en marcha cómo podemos proponer crear otro plan y seguir creando protocolos y seguir creando

y más protocolos sin analizar y ver qué es lo que podemos mejorar

en aquellas decisiones que entre todos hemos tomado yo creo que no se trata de estar en contra de la literalidad del texto

cuáles son las razones para el voto en contra en este caso del partido socialista a la enmienda que ustedes han firmado

a la literalidad somos contrarios a seguir aplicando cosas sin analizar lo que ya tenemos creemos que el informe es bueno creemos que el informe es objetivo

hay que tener en cuenta que ha bajado el número de detenciones para acabar subiendo el número de imputaciones pero es verdad que el número de detenciones a mujeres es menor siguen acabo los protocolos se tienen en cuenta todo lo que tiene que ver con los cacheos el tema del idioma

en donde había más carencias era quizás en explicar el motivo de estar allí una mujer detenida en unas semanas se debatirá algo que tiene mucho que ver con esto la señora goirizelaia ha presentado algo muy relacionado con esta iniciativa

hoy estamos hablando y seguiremos ahondando en lo que tiene que ver con este tema pero concluyo diciendo que compartiendo la filosofía compartiendo la preocupación nuestros esfuerzos debieran estar en consensuar el modo de plasmar esas herramientas que queremos poner en marcha como digo

y de los partidos políticos que representamos a esa sociedad sin dejar de reconocer lo que el movimiento feminista ha conseguido y continuará consiguiendo en este tema desde luego nosotros no renunciamos a aquello en lo que nos comprometemos como es la ley contra las violencias machistas que podrá ser posible en euskadi si todos trabajamos
y decir que aunque vamos a votar en contra decirle que no estamos en contra del tema y que espero que sigamos trabajando para acabar encontrándonos nada más muchas gracias eskerrik asko

el grupo de trabajo departamental realiza anualmente el seguimiento de ese plan

en el aplicativo de emakunde del cual también estuvimos hablando en otra proposición no de ley

que afectaban pues entre otros también a los planes la academia de arkaute como organismo autónomo también tiene su propia evaluación de su plan

con un plan actualmente en vigor para el periodo dos mil diecisiete dos mil veintiuno le voy a decir más el veintidós de mayo pasado el consejo de dirección de emakunde aprueba el séptimo plan de igualdad dentro del cual

ya ha aprobado las prioridades de esta legislatura y está trabajado en el plan

que ira acorde a las directrices que se marcan en ese plan de emakunde

un grupo de composición paritaria y que trabaja coordinadamente con el grupo de trabajo del departamento y además una miembro de ese grupo de la ertzaintza se dedica íntegramente a la dinamización de acciones en pro de la igualdad dentro de la ertzaintza jatorrizko ekimenean aipatzen duzun

forma y se forma y le puedo contar acciones de formación impartidas por la ertzaintza hasta un total de dieciocho con mil trescientos diecinueve participantes y también se forma

con más de novecientos setenta participantes se ha abierto también un proceso de reflexión sobre las contradenuncias que era una de las cuestiones sobre las que se incidía en el informe se está trabajando sobre este tema sin que sea entiendo una cuestión meramente policial pero bueno que igual transciende más al ámbito jurídico pero se producen las contradenuncias

pero informan también a los denunciantes y denunciados de que esta denuncia cruzada se ha producido y además le puedo decir

se garantiza por el equipo responsable de ese proceso de que esa información se da polizia politika batzuk ere ari dira berraztertzen ertzaintzan eta adibidez

buenas tardes a todos bien yo creo que es verdad que la preocupación por este tema no debiera ser al menos o parecer que es monopolio de algunos grupos porque creo que es algo general de todos porque efectivamente tal y como ha dicho la señora arana en el año dos mil tres la asamblea general de naciones unidas en su resolución

en prisión incluidos los hijos de las mujeres que se encontraban en la misma con el fin de identificar los problemas

se dio un siguiente paso con la aprobación de las reglas para el tratamiento de reclusas y medidas

un cuerpo normativo que estaba formado por setenta reglas que abarcaban desde principios generales a otros más específicos como reglas mínimas para el tratamiento de

con respecto a la situación de especial vulnerabilidad que atraviesan las mujeres privadas de libertad pero señalar que parece

nada y decir que tanto en el resto de españa como en euskadi sí existen actuaciones por ejemplo y en el resto de españa por decir un ejemplo la policía nacional ha creado

de género también ha organizado por ejemplo un curso para la igualdad del género a la policía nacional que establecen la necesidad de formar agentes de escala ejecutiva

institucionales con otros organismos externos con competencias en la materia

hay que señalar que los poderes públicos vascos deben incorporar la perspectiva de género en todas sus políticas y acciones de modo que establezcan en todas ellas el objetivo general de eliminar desigualdades y promover igualdad entre hombres y mujeres así señala emakunde que integrar la perspectiva de género supone

dirigidas a eliminar desigualdades y promover la igualdad en todas las políticas y acciones a todos los niveles y en todas las fases de planificación ejecución

nacional internacional y la propia esta perspectiva de género debe incluirse en todas las políticas y por lo tanto también en las políticas de seguridad creo que hasta aquí y como le decía a la señora rojo estamos todos de acuerdo que la preocupación común y que creo que la actuación

departamento de seguridad es algo que todas las que hemos intervenido defendemos la iniciativa lo que

de plantearse la misma la proponente la experiencia en el trabajo de experiencia de la detención policial de las mujeres

en la comunidad autónoma del país vasco cuyas las conclusiones

en la comisión de seguridad de este parlamento lo que pasa es que yo oyendo algunas de las intervenciones que he oído aquí creo que oímos cosas distintas o hemos leído cosas distintas en el informe verdad porque en dichas conclusiones se señaló en primer lugar efectivamente que el número de mujeres detenidas es mucho menor

según datos de la ertzaintza que además coinciden con los datos de policías locales del total de las personas detenidas o imputadas efectivamente

solo el diez coma nueve por ciento corresponden a mujeres aunque es verdad que los últimos años el número de detenciones porcentualmente de mujeres

a los hombres y la mayor parte de las detenciones de las mujeres yo es que aquí

están provocadas por delitos contra el patrimonio que yo creo que contra el patrimonio

no lo veo pero bueno hablábamos de las reglas de bangkok pero también hay que señalar que van referidas fundamentalmente a mujeres

y no podemos olvidar que en cualquier caso una cosa es la estancia en prisión

indica en euskadi no viene a durar más de veinticuatro horas también el propio trabajo

durante las distintas fases de la detención para garantizar su calidad y la duración mínima en todo

un efecto persuasivo en favor de evitar las detenciones y en su caso primar las imputaciones y lo ve como claramente positiva esta tendencia porque ha hecho que disminuya el número de detenciones y por lo tanto el número de personas y el número de mujeres evidentemente que transitan en los calabozos policiales es verdad que establecía como una de sus cuestiones quizás negativas el que dada esa rapidez a veces podían no entender

los motivos de la detención que en cualquier caso le son explicados que un hombre y si hay aspectos de mejora en ese sentido pues habrá que introducirlos y creo que la ertzaintza los introducirá pero ya digo lo mismo para un hombre que para una mujer

aporta conclusiones muy interesantes y que yo creo que deben ser tenidas y que van a ser tenidas en cuenta

su plan de igualdad plan que además se verá afectado como también se ha dicho aquí porque hace muy poquito en este mes de mayo

de euskadi del que después dimanarán o se tendrán que modificar el resto de los planes de los departamentos porque cada departamento tiene su propio plan de igualdad

como se ha dicho aquí algunas de esas conclusiones llevadas a la práctica tienen su dificultad

que se pueda mejorar que siempre hay ámbito de mejora seguramente pero la tiene la tiene existen como he dicho antes

no solo para en caso de las detenciones de las

yo me pregunto si ese tratamiento que se intenta dar

dar a las mujeres si más que introducir la perspectiva de género no estaríamos

que las propias redactoras del informe decían que las detenidas ese exceso de paternalismo que a veces había con las propias mujeres yo creo que a veces la neutralidad en una detención no es algo o sea

no es algo negativo porque a veces introducir esas diferencias lo que puede llevar a un paternalismo que también era rechazado por las redactoras informe como digo nosotros consideramos que las aportaciones son interesantes pero que en cualquier caso algunas de las cuestiones se plantean como si fueran novedosas cuando creemos que ya se están realizando y que desde luego no veíamos la necesidad de un plan específico sino dentro de ese plan incluir esas

y las policías locales dirigidas a agentes destinadas a explicar por qué y cómo integrar la perspectiva de género dentro de la policía en la que se analizaban precisamente las experiencias de distintas

que pronunciar cuando venga la iniciativa a la que he hecho referencia a la portavoz de eh bildu

por ejemplo la de la recomendación de que hubiera una mujer agente en todas las comisarias

se van a dar dificultades para cumplirlo hasta que no alcancemos un número de mujeres en la ertzaintza equiparable al de hombres porque esa garantía podría ir en contra de las propias mujeres agentes y de la propia carrera profesional de las propias mujeres agentes con relación a la cuestión de las denuncias cruzadas y al efecto perverso que pueden tener y que podemos estar de acuerdo con ello yo creo que

de una pura cuestión de la detención en ese momento por qué porque se lo han dicho aquí cuando

va a denunciar a la persona que supuestamente el ha agredido y le ha presentado una denuncia un agente de la ertzaintza tiene por obligación recoger esa denuncia

un planteamiento que como digo sería más dentro del ámbito judicial o del ámbito legislativo para evitar precisamente ese efecto perverso que pueden producir las denuncias cruzadas y bueno yo creo que eh bildu voy acabando señora presidenta si ya en el planteamiento de la iniciativa yo creo que la intervención aquí

a hablar de las bases sociales y de la eliminación del machismo que creo que trasciende sinceramente de la iniciativa concreta que aquí nos traía a debate

tengo que coincidir con la señora berasaluze que dice que estando ce acuerdo como estamos este grupo indudablemente con la inadmisibilidad absoluta de la existencia de malos tratos o abusos sexuales da la sensación con la enmienda que ustedes han planteado que esto es una práctica habitual

y todo lo contrario existen protocolos de actuación en la ertzaintza como en el resto de las policías precisamente para garantizar que el trato con todas las personas detenidas

eskerrik asko de nuevo señora rojo

una pena que estando tan de acuerdo tan de acuerdo

por sus palabras me haga referencia a un texto que no le gustaba o que había matices mejorables

desde el principio y creo que ya nos van conociendo

de llegar a acuerdos de verdad que todavía nos queda capacidad para asombrarnos y de verdad que el pnv se agarra al piloto automático y no lo sueltan

como platos si todo parece que se está haciendo

cosas repito que podían haber propuesto

nadie a dicho que la ertzaintza no tenga un plan de igualdad estamos diciendo que dentro de ese plan hay que hacer un plan para valorar

que hay un problema y que hay personal de la policía que nunca se ha planteado si está atendiendo o no desde una perspectiva de género y atendiendo o no a las mujeres como se debe

con su circunstancia en el mundo de las mujeres y las feministas no paran de plantear nuevo debates nuevas propuestas y ustedes a lo suyo con el piloto automático

las cosas que hacen y repiten una y otra vez una y otra vez y que a la vista de los datos y de los informes no son suficientes

para que lleguemos a poder erradicar mejorar y superar el marco actual

miren hay bibliografía extensa les cuento que la criminología feminista es ya una corriente

también les cuento que hay iniciativas en diferentes lugares del mundo muy interesantes sobre esto que proponemos hoy aquí

y ustedes haciendo malabares para tirar balones fuera y seguir con el piloto automático les están pasando por encima la segunda la tercera la cuarta y todas las olas del feminismo y ustedes ni se enteran

me preocuparía yo me la miraría el grupo popular señora llanos ni siquiera ha presentado enmienda

seguridad y sí le interesan solo cuando puede hacer sensacionalismo y populismo

no le han dedicado ni un segundo a este problema y consideramos que en ese informe hay muchas cosas de las que

por no hablar del pnv y su falta de voluntad política para llegar a un acuerdo ni una contrapropuesta ni una sola contrapropuesta y eso que a la señora berasaluze le comenté que estaba dispuesta y esperaba

y que esperaba que me hiciese alguna contrapropuesta y pudiesemos hablar

tic tac tic tac sigo esperando lo entiendo su piloto automático

para que si le apoya el pp ya ni se molesta en negociar solo lo hacen cuando se quedan fuera del tablero de juego señora

siempre son y las de su partido seguir haciendo continuar haciendo lo que ustedes dicen que hacen

y toneladas de autocomplacencia nosotros les proponemos debatir y llegar a acuerdos

o esta frase no estamos de acuerdo con ella es que de verdad cero propuesta el piloto automático que por cierto nos hemos dado cuenta de que el piloto automático sirve para las políticas de emakunde en los periodos dirigidos por el pnv

que ignoran cuando no rechazan por ejemplo la publicación sobre brecha salarial que hizo emakunde en ese tiempo fue motivo

si se recuerdan otras veces tienen la costumbre de proponer cositas puntos aislados para salvar la situación y para maquillar sus omisiones inaceptables pero es que además

en este caso como en otros muchos ustedes se saltan sin ninguna vergüenza la normativa de recomendaciones internacionales lo mismo el convenio de estambul

y también se salta las directrices y políticas de emakunde del instituto dirigido por ustedes entonces nosotras ya no sabemos si prestar atención a lo que dice

o a lo que dice y escriben otras personas del gobierno que ignoran sin complejos a su compañera de gobierno le recuerdo que emakunde fue quien financió este estudio y por lo tanto promovió que se abra la caja de pandora y la propia landaida explicó durante el acto de presentación que las conclusiones del estudio

evidencian diferencias de género no lo he dicho yo lo ha dicho la señora landaida

identifica y resuelve y ahora quieren meterlo en el cajón piloto automático les pido que

con ese estudio y ese problema que está detectado y documentado y no me vengan con ninguna de las tres opciones

cositas para maquillar o dejar las políticas de igualdad en la esquinita la enmienda que ustedes van a aprobar son cositas para maquillar un problema mucho más amplio y profundo no nos vamos a quedar tranquilas ni apaciguadas queremos propuestas ambiciosas

queremos ampliar la mirada propuestas integrales y no solo un parche detrás de otro y ya acabo queremos planes claros con responsables plazos objetivos
metas indicadores y recursos claros ni más ni menos eskerrik asko eskerrik asko

un número menor de mujeres detenidas es la causa del problema hau da esaten ari gara inbisibilizazio arazo

estamos de acuerdo señora arana con el objetivo que usted plantea pero esta iniciativa entiendo que nace de la presentación de ese informe ese día de marzo

para realizar ese informe se trabajó con mujeres con abogados

y ustedes proponen la creación de cosas que ni ese informe dice

y a partir de las propuestas de ese documento poner en marcha medidas si es que hay que ponerlas porque lo que no podremos negar es que se están haciendo muchas cosas

debe invadirlo todo en todas las políticas y yo creo que es una labor que está haciendo el gobierno un compromiso que también adquiere emakunde porque

un planteamiento contradictorio entre lo que planteamos aquí las parlamentarias que sostenemos al gobierno y lo que dice la directora de emakunde pero creo que el problema quizás

del discurso no en el contenido del mismo eso es

lo que ha pasado aquí y luego señora olabarrieta no se puede concluir que la bajada de detenciones a la invisibilización no se puede concluir y usted ha querido rebatir el tema que creo que le hemos dicho algunas de que el propio informe reconoce que se han bajado detenciones de mujeres para que haya más imputadas

que no debiéramos unir y como digo creo que hay muchas cosas que se podían hacer y creo que la negativa a votar a favor

proponen un subplan del plan un subplan del plan señora arana es dentro del plan

complicado primero de elaborarlo para el propio gobierno complicado de gestionarlo y luego complicado de ver exactamente las políticas que se logran a partir de la creación

exigir el cumplimiento íntegro de lo que hoy tenemos por lo tanto creo que el informe es positivo

es que aunque queda mucho por hacer no está todo tan mal que hay que mejorar por supuesto en esto y en todo y creo como digo que la perspectiva de género debiéramos de

pero creo que sí se han hecho muchas cosas por tanto no es que no estemos de acuerdo ni en la preocupación ni en lo que se quiere lograr ni en la necesidad de poner en marcha muchas cosas

de intentar plasmar lo que ustedes pretendían hacer nada más muchas gracias

señora arana mire me parecen unas cuestiones lo suficientemente serias para no polemizar en exceso en esta tribuna

normalmente le veo desde mi escaño hoy me toca debatir con usted y está usted siempre con su erre que erre erre que erre dándonos lecciones a todos porque proponga lo que proponga

que lo copia y pega para cada uno de los debates que trae aquí y no le voy a permitir que me hable ni de piloto automático

que han estado en emakunde representando al partido nacionalista vasco ni nada de eso vamos o sea y balones fuera nunca no echamos eh y las lecciones

la perspectiva de género en todas las políticas que el partido al que represento lleva a cabo

es cierta o sea es así autocomplacencia también

le he contado aquí es lo que ya se está haciendo y también le he dicho que siempre se puede hacer más evidentemente y su propuesta original y nuestra enmienda tampoco distaban tanto

porque dentro del plan de igualdad nosotros sí hemos propuesto que se inserten las conclusiones que se han sacado del informe que aquí creo que era el origen de su propuesta porque cuando se presentó aquí el informe también yo lo valore positivamente y también cuando se hablaba del menor número de mujeres que pasan por comisaria comparativamente a los hombres sí que puede ser que eso haga

de la presencia de la mujer en una comisaria y que ese informe lo ha

cuestiones que pueden aportar y que se pueden mejorar el trato que se da a las mujeres

estoy absolutamente de acuerdo pero quizás yo creo que la divergencia hoy ha estado más en el contenido sino en las vías o en las formas entonces yo creo que hay que seguir avanzando el departamento de seguridad tiene el compromiso de seguir avanzando y creo

al punto al que ha llegado pero tampoco le voy a permitir que desde esta tribuna diga cualquier cosa

bien mire señora arana mire que usted y yo en muchas cuestiones somos coincidentes por eso y se lo he dicho antes creo que el monopolio sobre la igualdad sobre la perspectiva de género

no debiera ejercerse por ningún grupo tampoco se debieran dar pues eso lecciones

o a esta parlamentaria porque no ha presentado

una enmienda mire yo creo que si algo tengo claro es que le hago un marcaje al departamento de seguridad importante pero no en temas sensacionalistas creo que en casi todos vamos

pero lo que no voy a hacer tampoco es que si algo se está haciendo simplemente no reconocerlo es que

se presentó el informe del que por cierto yo de verdad igual es que es

pero decir que el informe cuestionaba el sistema sancionador como un instrumento de control social de la mujer yo eso esa conclusión del informe no la saqué ahora ya le digo que igual es por mi falta

interesantes yo hablé con agentes

efectuando detenciones cuando presentaron su propuesta y una propuesta más específica

yo se la llevé a distintos agentes y pregunté en distintas comisarías qué se hacía

que se planteaban se estaban haciendo probablemente con margen de mejora pero que además se solicita yo creo que porque al final los grupos que sustentan al gobierno en muchas ocasiones presentan enmiendas

al departamento de seguridad precisamente para que ese margen de mejora o esas actuaciones que pueden ayudar

a esa visibilización que ya hay visibilización de las mujeres pero a un incremento de esa visibilización y a un incremento de la introducción de la perspectiva de género

pero de ahí a empezar a hacer una serie de iniciativas como si no hubiéramos hecho nada como si partiesemos de cero como si aquí todo no se hiciese en este asunto concretamente determinadas cuestiones y luego

a meter en cada una de las propuestas algunas de las cuales creo que no se pueden realizar porque irían en contra de las propias mujeres en este caso de las agentes de la ertzaintza pero mire es que hay una que no me puedo sustraer dice en una de las cuestiones

porque es cierto que los estándares mínimos de aseo se han elevado de manera importante a lo largo de las últimas décadas supongo que eso para cualquier detenido hombre o mujer

y señala en ese informe que hay que aceptar que las mujeres en general por su condición de género suelen estar sometidas a una mayor vigilancia externa del aspecto físico

especial a las detenidas para que den más importancia a

en ese kit básico y yo a lo que me niego es a que si una detenida por ser mujer en el kit especial haya que darle

para que su aspecto físico se valore bien cuando tenga que comparecer ante un juez creo que eso desde luego hace poco

los medios de comunicación independientes han sido silenciados

su detención hace más vulnerables a las personas por las que luchaban

ninguna de estas personas ha hecho nada malo sin embargo sobre todos ellos pesan todavía cargos relacionados con terrorismo a pesar de que las acusaciones sean ridículas y faltas de fundamento ez dagoenez froga sinesgarri eta onargarririk